gracias señora presidenta buenas tardes lehendakari consejeros señorías

en este mundo de felicidad optimismo y color que nos vende se consienten actos que nos avergüenzan que quiere ocultar y que se producirán en unos días le hablo de los homenajes a etarras asesinos en serie el próximo sábado señor urkullu se realiza un homenaje a henri parot

en su espalda pero no en su conciencia pues no muestra arrepentimiento ninguno usted dice que el gobierno vasco no tiene mecanismos para prohibirlo en vox

para eso podrá contar con vox en todo momento nos pondremos a trabajar con ustedes para dejar de humillar a las víctimas

mecanismos necesarios para frenar los ongietorris pero su partido el pnv

se opusieron junto con podemos y bildu y este señor lehendakari

en su balance del primer año de la legislatura vox siempre se enfrenta a ellos

un vasco como muchos que planta cara a la violencia en la calle no detrás de un micrófono como usted

para eliminar cualquier acto de humillación a las víctimas y de exaltación del terrorismo pero después de ser promotor directo del cordón antidemocrático que aplica a vox cómo vamos a unir su voz a la nuestra si nos han puesto una mordaza debería plantearse rectificar

usted define esta cámara como el foro de la representación el diálogo y el acuerdo no olvide que usted también es el lehendakari de dieciocho mil vascos que votaron a vox usted quiere invisibilizar

de vox ocultándonos como grupo mixto

esta parlamentaria es de vox por qué no comienzan a llamar a las cosas por su nombre

vox a los ongietorris homenajes a los terroristas nosotros estamos orgullosos de lo que representamos principios honestidad

con los diferentes estados de alarma inconstitucional que se impusieron en toda españa con su voto favorable usted dirá que ha hecho una gestión ejemplar pero cuatro mil ochocientos sesenta y tres vascos han perdido su vida

cientos de empresarios y autónomos están en la ruina y obligados a echar los candados de sus negocios puede comprobarlo con el aumento de las listas del paro hablamos de familias vascas

para poder vivir señor urkullu no es momento de sacar pecho sino de arrimar el hombro hágalo por esos vascos que lo necesitan que no quieren medallas en el parlamento vasco sino un plato de marmitako en sus mesas le recuerdo por ejemplo su gestión de la hostelería

ahora con restricciones todo eso sin ningún informe sanitario que lo avalase los hosteleros están hartos y desconfían de su gestión curiosamente lo mismo que hacen los jueces que le han dicho que deje de dar palos de ciegos y que las medidas que tome las avale con informes

usted intenta burlarla de manera constante pero ahí se encuentra con vox que recurriremos por ejemplo esta ley antipandemia para garantizar que el gobierno vasco actúa de acuerdo con la legalidad y no impone el autoritarismo

no se apropie por ejemplo de logros que no son suyos como el avance de la vacunación en el país vasco

no se trata de reconocer su esfuerzo ante la galería se trata de respetar sus puestos de trabajo y no mandarlos a la cola del paro cuando amenaza una sexta ola por cierto es responsable

a hordas de impresentables dispuestos a todo para seguir con su fiesta en cada actuación se veían superados por la masa actuaciones de alto riesgo que ustedes deberían haber evitado porque los botellones eran ilegales ya antes de la pandemia

más información veraz y menos propaganda en resumen menos imposición los vascos necesitamos recuperar las libertades que nunca debieron quitarnos necesitamos acabar con el autoritarismo injustificado y reaccionario de este gobierno

hablando de autoritarismo lo hemos visto también en los fondos europeos necesitamos más transparencia en la gestión de esa ingente cantidad de dinero que va a llegar de europa

debe explicarnos cuáles han sido los criterios de decisión de los proyectos en los que va a invertir nuestros impuestos debe explicarnos si obedecen a criterios sociales y económicos

hosteleros restauradores turismo ocio nocturno muy necesitados de ayudas e inversiones que les permitan mirar hacia el futuro con cierto optimismo

pero que ven como algo lejano y que no saben si llegará a sus manos en su día criticamos el proceso por el que este gobierno apostó para identificar los proyectos estratégicos la contratación casi de urgencia de una conocida consultora y la nula participación del tejido económico en la selección de proyectos recuerda el

hablaba de diálogo y acuerdo y la única aportación que admitió fue del pp por cierto fue una aportación ortográfica pero usted desplegó

diálogo y acuerdo aunque la realidad sea diametralmente opuesta

está muy equivocado estaremos vigilantes para que ustedes cumplan aquello que han prometido y los fondos europeos lleguen a su destino sin que euro se quede por el camino no permitiremos que se apropien de ellos planes corruptos y estómagos agradecidos y hablando de usurpaciones le informo que el informe que han bautizado como la erosión silenciosa

en vox vigilaremos que la disputa entre su partido el pnv y sus rivales eh bildu

a la hora de reivindicar su república vasca independiente va a frenar esa sed insaciable de autogobierno por la que rivalizan pnv y eh bildu

y sacar al país vasco de europa aislándonos del mundo pero la pandemia ha venido a mostrar las debilidades del estado de las autonomías

señor urkullu usted se retrae y deja pospuesto el nuevo estatus político y lo hace porque los datos de la pandemia y la violencia que forman parte del adn de su rival político eh bildu

su socio el pse empieza a mostrar las uñas eso sí perfectamente cortadas e inofensivas y los socialistas dicen que usted no es claro una pantomima

de gobierno que esto iba a ocurrir y con quién iban a gobernar y ahora nos quieren hacer creer que no saben si se enfrentan a su socio pnv o a su rival eh bildu

más centralización competencial más colaboración entre comunidades hermanas los mismos privilegios para todos los españoles vivan donde vivan en cualquier parte del territorio avanzando unidos unidos venceremos todos los obstáculos y para eso tenemos que entendernos

la protección del puente que nos une el español y más aún con la reciente noticia del tribunal superior de justicia del país vasco de elevar al tribunal constitucional la posible ilegalidad de algunos artículos de la ley de instituciones locales

además de materializarse en el fracaso académico que solo lleva al país vasco a la pobreza y la precariedad los más perjudicados de este modelo impositivo del euskera son las familias más humildes que no pueden permitirse llevar a sus hijos a colegios o universidades privadas como hacen muchos de los políticos separatistas por otro lado pronto se cumplirá el año del relevo de la cúpula de e i te be y el ente público sigue siendo altavoz de postulados nacionalistas

martillo de infieles españoles y micrófono para quienes nos insultan y para quienes degradan todo aquello que suene a español que suene a españa la radiotelevisión de algunos pagada por todos y muy bien pagada parcial como pocas

el ejemplo más sangrante de gasto ideológico y partidista escondido tras la palabra pública señor urkullu

transparencia y autocrítica esa que echamos en falta en su discurso el país vasco necesita más españa y menos autogobierno gastar el dinero

necesitamos más democracia más igualdad de oportunidades recuerde que vox ama el país vasco al igual que ama y se enorgullece de españa no somos el enemigo somos vascos que luchamos por nuestro país y por nuestra tierra

mis primeras palabras están dedicadas a todas las personas todas las familias que han sufrido y aún sufren las consecuencias de esta terrible pandemia de la covid hemeretzi su dolor es el nuestro

quiero mandarles desde aquí nuestro respeto reconocimiento y nuestro afecto quiero también agradecer públicamente a todos los profesionales sanitarios médicos personal de enfermería farmacéuticos y a todos los profesionales de los servicios esenciales su dedicación por su esfuerzo

ojalá en esta legislatura que ahora cumple un año todos aquí nos esforcemos más por seguir su ejemplo señorías hemos sufrido mucho a causa de la pandemia un sufrimiento que nos ha afectado todos creo sin embargo que es el momento de mirar hacia adelante para ganar una recuperación que es el principal anhelo de nuestra sociedad

y también conscientes del camino recorrido sobre el que su mirada lehendakari y la de su ejecutivo debe ser más humilde y menos autocomplaciente

y a tantos portavoces de su gobierno permítame que le diga lehendakari con total respeto que a nuestro criterio la autocomplacencia define su actuación son un gobierno autosatisfecho cuando no triunfalista ya sé que usted se envuelve en ese tono de aparente humildad pero más allá de sus palabras los conceptos expresan

y esa autocomplacencia de la euskadi oficial contrasta vivamente con la euskadi real que lo sigue pasando mal muy mal en el día a día

pero ha sido un año de pandemia y de más cosas si hoy debatimos lo que se suele llamar el estado de la comunidad autónoma parece claro que ese estado no es bueno

la caótica gestión en algunos aspectos una lucha marcada por las múltiples contradicciones que ola tras ola

y con las máximas restricciones y con graves consecuencias económicas y sociales también porque asistimos a un impacto brutal sobre economía y empleo su autocomplacencia

el peor gobierno de nuestra historia democrática en españa alianza que nos presentan como si fuera un chollo para los vascos y cuando ha tenido tensiones

desde la autocomplacencia es imposible que reconozcan la dejación de algunas responsabilidades del departamento de seguridad

porque este ha sido también el año del envalentonamiento de los enemigos de la libertad en euskadi

y mofándose de los valores democráticos hoy en euskadi se sigue acosando y agrediendo a ciudadanos por sus ideas o se sigue señalando con el dedo y lo justifican los mismos que nunca han condenado el terrorismo de eta por más que se sienten en las instituciones

no basta con palabras su gobierno debe hacer más y pasar a la acción se les ve autocomplacientes en la falta de transparencia rechazando comisiones de investigación incluso en esta cámara frente a la corrupción el clientelismo o los escándalos

como el de las consultoras que tantos interrogantes ha abierto sobre el modo de funcionar nuestra administración y en el que tan pocas respuestas ha dejado a este ejecutivo ejecutivo

no ha asumido ninguna responsabilidad política por la catástrofe

con una trama que alcanza ya los veinte investigados

se vuelve a hablar de planteamientos de ruptura de quiebra de la legalidad democrática y de la convivencia lo hacen en términos de planes o replanes

que nada sirven al mejor futuro de la sociedad vasca del siglo veintiuno y solo la autocomplacencia también explica que en tan pocos meses

a aplicar un rodillo parlamentario que desprecia la mano tendida que le hemos venido ofreciendo desde nuestro grupo

lo hicimos también con más de ochocientos enmiendas en los presupuestos

su comportamiento ha sido insatisfactorio en esta materia lehendakari pero hoy volvemos

la normalidad la normalidad en todos los sentidos garantizar la seguridad y las libertades recuperar la actividad y el empleo y ganar el futuro desde la estabilidad y la confianza lo haremos por sentido de la responsabilidad por compromiso con los vascos que nos exigen trabajar mirando al futuro y pensando en el interés general de nuestra sociedad

la pandemia lo ha ocupado todo y nos ha ocupado a todos en este primer año de legislatura y si mala fue la gestión de su gobierno antes de las elecciones

afrontaron mal y tarde la primera ola y han seguido renqueantes después lo característico ha sido la autocomplacencia la falta de transparencia

a un diálogo de interlocución con los representantes de todos los ciudadanos la pandemia ha terminado de enterrar el mito de la buena gestión del pnv porque su gestión

en algunos momentos pudo parecer que todo se limitaba a criminalizar a la hostelería

que se acabó revelando como inoperante pero rechazaron pactar una ley antipandemia nacional y finalmente se vieron enfrentados a la justicia

los vascos nos hemos visto en situaciones comprometidas a menudo acosados por los peores indicadores de toda españa y buena parte del último año el protagonismo ha sido para escándalos de vacunaciones irregulares y relevos en el organigrama del departamento

a las situaciones han marcado su trayectoria en todo momento y si había alguna duda

en plena quinta ola de la pandemia y en un mar de contradicciones porque este ha sido

del galimatías a la hora de aplicar la orden para atajar los botellones nocturnos algo para lo que los ayuntamientos ni tenían medios ni se les proporcionaron

su compañera en plentzia el verano en el que se echaron en falta las campañas de concienciación dirigidas

que su gobierno rechazó cuando las propusimos en la ley antipandemia o en debates aquí en la cámara

ha habido de todo y mucho inexplicable a mediados de julio el departamento insistía en la vacunación de jóvenes y embarazadas pero la página web de su gobierno desaconsejando el veintitrés de julio la vacunación de esos colectivos y solo se corrigió cuando nuestro grupo lo denunció públicamente luego nos han acusado de desinformar ustedes dicen una cosa y la contraria y los que les informamos por avisar somos nosotros curioso

también tuvieron que rectificar en la vacunación de menores por año de nacimiento porque estaban vacunando a quienes todavía no habían cumplido los doce años es decir a quienes no había garantía de que se pudiera vacunar de forma segura a finales de junio recordaba usted lehendakari

hizo bien hizo bien pero a las veinticuatro horas el pnv se abstenía en ese mismo tema en el congreso de los diputados lo recordará claro que también votaron a favor en el consejo interterritorial de salud de realizar

a los trabajadores de las residencias y el trece de agosto anunciaban que no las aplicarían en euskadi el cinco de agosto se calificaba de situación límite la que vivía la atención primaria

en la falta de rastreadores y la incertidumbre sobre la vacunación de los escolares antes del comienzo del curso

la mayor fuente de contagio en fechas de plenas vacaciones y no fiestas y ante todo esto la señora consejera

tomaba otras decisiones incomprensibles por ejemplo desmantelar

en una ciudad con la mitad de ambulancias de las que recomienda la organización mundial de la salud o no querer solventar la insuficiencia de ambulancias medicalizadas en esta provincia en álava y debo decir que cuando por fin pudimos oír de nuevo a la señora consejera asistimos a un ejercicio de escapismo político coronado por una alarmante falta de autocrítica y parece que solo con lo que he relatado algún motivo de autocrítica

el progresivo logro de los objetivos de vacunación o la evolución de la incidencia de la pandemia

a los vascos la caótica gestión que viene haciendo este gobierno

se ha caído para siempre el mito de la buena gestión del pnv porque los vascos ahora estamos vacunados contra la pandemia y también contra la propaganda de la buena gestión del pnv

la pandemia sigue entre nosotros y la caótica gestión de la vacunación y las sucesivas olas de la pandemia no puede repetirse necesitamos una administración eficaz y eficiente

a planteamientos más abiertos más dialogantes en busca como decía

porque la pandemia no puede ser la excusa para la no normalización hemos planteado muchas iniciativas parlamentarias desde mi grupo que apenas han merecido la atención de este gobierno

ceñidas al ejercicio de nuestras competencias para ganar en eficacia y eficiencia

para evitar la inseguridad y los revolcones de la justicia a su gestión o para tratar de tomar la iniciativa ante la situación de las residencias y la necesidad de un replanteamiento

y el interés de nuestra sociedad requiere de una mayor receptividad de su gobierno a planteamientos que reitero

y la normalización de la vida de los vascos en todos los ámbitos

donde estamos y cómo afrontamos los vascos el futuro ya hemos visto que la pandemia

pero la pandemia tiene además una importante incidencia económica y social que solo ahora comienza a ser evidente y no somos una isla los datos están sobre la mesa los conocemos todos fíjese

superior al tres por ciento la mayor en cinco años que devora salarios y pensiones

de estas últimas una situación del empleo que ustedes han valorado de modo triunfalista ignorando la realidad situación que mejoraba poco a poco en junio es verdad

menos de la mitad de la media nacional pero que tras el verano presenta el mayor repunte de paro de toda españa una cifra de más de ciento veintidós mil parados en agosto

con la mayor destrucción de empleo en proporción a la población de toda españa

es decir uno de cada diez bajas del total nacional se ha producido aquí en el país vasco en euskadi por no hablar

de comercios o de la cifra de trabajadores autónomos que siguen cayendo mientras crece en el resto de españa indicadores todos ellos que no parece pueden recuperarse en poco tiempo todo esto en el agosto más positivo para el empleo en el conjunto de españa que se recuerda no está la cosa para autocomplacencias ni triunfalismos como hemos escuchado esta mañana tampoco invitaría desde luego el precio desbordado de la electricidad superando

un castigo más para las familias vascas empresas hostelería y comercios que el gobierno del señor sánchez su socio

es incapaz de atajar ni siquiera de abordar cifras desconocidas para los últimos años también en el precio de combustibles gasolina butano y muy especialmente el gas

de aguante de los vascos o el estrecho margen entre la recuperación y el cierre en el que hoy se mueven muchos pequeños negocios aquí en euskadi y no pocas empresas de todo tipo

y eso no son buenas noticias todo ello son los indicadores de una grave crisis que todavía no hemos superado de hecho con la llegada del otoño podríamos ver estancarse o retrasarse la recuperación según muchos expertos como le he recordado

incapaz de la nación está el señor sánchez la conclusión de sánchez en su regreso triunfal de vacaciones es que estamos mucho mejor que en septiembre del dos mil veinte y usted lehendakari casi al alimón vendió optimismo económico para los próximos meses y la señora mendia destacaba la positiva evolución del empleo

fueron temporales siete de cada diez nuevos parados menores de veinticinco años son mujeres y la cifra de desempleo juvenil ha crecido un quince coma cinco por ciento eso sí a usted y su gobierno estas cifras no les afectan porque ha aumentado el número de altos cargos en un veinte por ciento

si de verdad cree que se puede faltar tanto a la verdad ante los ciudadanos porque el fracaso del gobierno sánchez podemos es patente cada día

cogobernanza que consiste en pasar la patata caliente a las comunidades autónomas en todo momento un fracaso que el pnv y su propio gobierno señor urkullu como socios de sánchez y el psoe en madrid y vitoria comparten plenamente

los de las recetas populistas las subidas de impuestos y los derechos más para ellos que para los demás

solo cabe esperar lehendakari una vida más cara y más difícil para los vascos en estos próximos meses

ganar esa recuperación cuanto antes requiere lo contrario

una ciaboga que nos aleje de las políticas de sánchez y de podemos un cambio de rumbo para resintonizar con el interés general o lo que es lo mismo menos postureo cartitas fotos y propaganda y poner el acento en la creación de empleo la estabilidad

en la gestión seria y responsable de los fondos públicos y creo hoy tiene usted una magnífica ocasión para ser claro en esta materia

pero es fundamental fundamental que dejemos de ir de la mano de sánchez

es incompatible con el interés de los vascos porque ese futuro de prosperidad que todos deseamos se aleja se retrasa cada día que ustedes mantienen su aval a sánchez

debemos centrar nuestros esfuerzos económicos en la reactivación hosteleros pymes autónomos todos los sectores a los que ustedes se han enfrentado de modo tan injusto y siguen precisando apoyo y ayudas estas resultan escasas dada

porque siguen sumidos en el desconcierto al que su gobierno tanto ha contribuido y desde las empresas todavía con la

o el repunte del absentismo laboral se ven ya nuevas complicaciones en el horizonte

lehendakari debería ponerse a trabajar cuando los empresarios hablan de atraer y retener talento de la amenaza que representa nuestra menguada demografía para el relevo generacional

o de la necesidad de recualificar a una parte importante de personas activas en euskadi el próximo presupuesto debe poner el acento en las ayudas a la reactivación

lejos de su tierra lamentablemente detener la fuga de talento

tiene mucho que ver con un futuro de mayores oportunidades para nuestros jóvenes queremos sumar para no dejar a nadie atrás como le gusta decir a sánchez pero lo cierto es que no tienen ustedes prisa en reformar lanbide ni la renta de garantía de ingresos y esperamos el proyecto de ley

en legislatura porque queremos ayudas justas para tantos en euskadi que lo siguen pasando mal

en hechos puede contar con nuestro apoyo para lograrlo porque a día de hoy las ayudas directas del gobierno de sánchez al que apoyan son un fracaso poco más de cuatro mil solicitudes a causa de las condiciones exigidas

va a paso de caracol si es que va y el plan renove de automoción

lo han aplicado luego de forma insuficiente e ineficiente más acuerdos para una mayor eficacia lehendakari y eso será especialmente importante en la gestión de los proyectos

más acuerdos para impulsar una reforma fiscal que refuerce la recuperación como están haciendo otras comunidades autónomas el concierto económico debe ser una herramienta clave para rebajar impuestos y ganar velocidad en la recuperación

al esfuerzo de gastos que realizamos hemos recibido noticias preocupantes que confirman el error dramático para toda una generación de alumnos y docentes de subordinar la educación a la euskaldunización el desplome de resultados de calidad de capacitación no solo lingüística es necesaria una reflexión a fondo y una rectificación y nosotros estamos dispuestos a acordar aquí con las juntas generales en favor de las familias las empresas y los autónomos vascos

deterioro de los derechos fundamentales de la convivencia de las libertades garantizadas por nuestra constitución

contra quienes desean ejercer sus libertades por parte de quienes nunca respetaron los derechos humanos ni han condenado el terrorismo y también por parte de nuevos grupos bandas organizadas que pretenden apoderarse de las calles lo que digo tiene expresión concreta en dos mil veinte el país vasco

a la que quizá no se ha dado suficiente importancia nos situamos en primer lugar entre las comunidades autónomas en delitos de odio y nosotros no creemos que esto pueda ser considerado

hace falta un esfuerzo específico para combatir con unidades especializadas de la ertzaintza esas bandas a veces no tan juveniles

a la izquierda abertzale bildu desde no comprometerse en verdaderos delitos de odio

hasta no combatir el acoso a otros ciudadanos las reiteradas palizas a militantes de partidos políticos democráticos comenzando por los jóvenes de nuevas generaciones del partido popular

se han desmarcado de cualquier condena en cualquier institución de una lista larga de agresiones y actuaciones incompatibles con los valores de una sociedad democrática al contrario legitiman toda esta violencia amenazas y acosos es manifiesto que no están dispuestos a recorrer

les basta con haber llegado a la legalidad estar en las instituciones

y como sostienen al gobierno se cobran cada viernes en evidente pago de un precio político el acercamiento de unos cuantos terroristas condenados por la justicia esos cinco a la semana que acertadamente dijo en esta tribuna

desgraciadamente los ataques a la ertzaintza cada vez más violentos

con pandemia o sin pandemia han sido noticia casi cada día durante este verano

recurre al puro sarcasmo hablando de altercados antisociales ocio neoliberal y otras lindezas mientras los sindicatos policiales fíjese piden ayuda al ministro grande marlaska quién lo iba a decir

relación con el departamento y nuestros policías se sienten postergados en su carrera profesional respecto a otros colectivos de funcionarios

lehendakari la ertzaintza precisa un apoyo sin fisuras que debería llegar de esta cámara

a esas agresiones y hacer cumplir la ley medios materiales suficientes personal y dispositivos adecuados que es lo que ha faltado durante los últimos meses no porque lo diga yo lo dicen los agentes de la ertzaintza que necesitan algo más que palabras porque todos sabemos

hay que señalar a los responsables lehendakari no solo cuando hablan de miserias o la moralidad del lehendakari hay que exigirles responsabilidad en todos los ámbitos hay que ponerles ante el espejo en las instituciones a partir de principios y valores democráticos que la inmensa mayoría de los vascos compartimos desde enero que el señor ortuzar lo minimizaba hablando de la mozkorra borroka hasta que han puesto nombre y apellidos a los responsables en septiembre han pasado ocho meses de perfil para no incomodar a bildu hay que denunciar y combatir el discurso del odio

por cierto he echado de menos en su discurso de hoy y lo lamento que usted haya obviado y no ha hecho mención alguna de los ataques

y sus hechos y sus hechos lehendakari consisten en un proyecto de ley de memoria histórica y democrática que blanquea a eta y olvida partes importantes de nuestra historia es decir es desmemoriado y antidemocrático en algunos aspectos o en un plan de convivencia

hay que pasar a la acción y esto no es pasar a la acción así no se combate el rebrote de la violencia en nuestras calles

ni se garantiza la convivencia ni se sirve a una sociedad democrática una sociedad democrática

multiplicarse las humillaciones a las víctimas del terrorismo otegi ensalza terroristas día sí y día también cuando no plantea lisa y llanamente la amnistía

está ejecutando uno a uno los doscientos cincuenta recibimientos homenaje a terroristas que prometió él en su día de nada ha servido el acuerdo del parlamento vasco que presentó el partido popular en el año dos mil diecinueve se acuerda como de nada sirve recordar lo hizo en agosto el lehendakari

a quienes nunca se han arrepentido de sus crímenes si después no se obra en consecuencia para pasado mañana está convocado

de borrar de un plumazo el pasado y hacer olvidar los crímenes de medio siglo de terrorismo en esta tierra

un homenaje tan injusto cruel y obsceno son sus palabras lehendakari como todos los anteriores

y a tantas humillaciones de partidos antidemocráticos que siempre justificaron a eta y cada día homenajean a los terroristas

y negacionismos de todo tipo aquí nos enfrentamos a demasiados negacionistas del terror de eta por eso necesitamos lehendakari memoria frente al blanqueamiento de los terroristas y sus crímenes dignidad

y justicia con mayúsculas con toda la convicción y la exigencia de la democracia y sus valores en vez de homenajes

que nunca se han arrepentido de serlo todo esto supone también esfuerzos compartidos por todos los demócratas tiene que ver aunque no quieran oírlo

un nivel de exigencia ética sobre bildu y quienes siguen sin condenar el terrorismo de eta ni renegar de su historia criminal mayor del que hemos visto en los últimos tiempos o la anterior legislatura mirando al futuro es imprescindible que la sociedad democrática vasca

ese objetivo también en esto le tendemos la mano tampoco creo que nadie dude

que es de lo que se trata en un debate de política general el ejercicio del autogobierno

mejor dicho en el modo de ejercer el autogobierno están muchas de las claves de este futuro

aportando confianza desde la responsabilidad y la estabilidad o puede dedicarse de forma irresponsable a agendas políticas ajenas al interés general de nuestra sociedad sembrando inestabilidad y desconfianza o lo que es lo mismo puede ejercerse

desde la exclusión la imposición y la unilateralidad y en esto lehendakari

para el futuro a la vista de lo que nos anuncian para las próximas fechas

dentro del marco constitucional se reforma y mejora

parece que tienen ustedes la tentación se barruntaba desde la investidura de jugar ahora con una mayoría pnv partido socialista para el día a día

para el día de mañana para impulsar ese famoso nuevo estatus en el que

se llama concierto político nuevo nombre para las más viejas ideas del nacionalismo que sigue sin comprender ni aceptar el carácter plural y diverso de la sociedad vasca bildu les ha tomado la palabra y ya se ha mostrado su disposición para impulsar un estatuto soberanista junto a ustedes

lo decía hace un momento que están crecidos que saben como saben ustedes que sánchez al frente del gobierno de españa es una oportunidad de oro para cualquier dislate

nunca habrá mejor ocasión que ahora esa ha sido la oferta de bildu una oferta basada en el acuerdo que alcanzaron con ellos la pasada legislatura en el seno de la comisión de autogobierno ahora les presentan la cuenta y nosotros lehendakari le exigimos claridad frente a esa oferta queremos saber si

al desatino de viejas obsesiones identitarias o si rechazarán ese ofrecimiento en nombre del interés general de esta sociedad porque la obsesión identitaria conduce a donde todos sabemos a la ruina a la catalana es decir

entre todos los vascos como vimos con el plan de ibarretxe es la vieja historia de quebrantar las opciones de futuro la prosperidad y la convivencia en el seno de sociedades plurales

ese camino que yo definía antes como el de la exclusión la imposición y la unilateralidad no nos hagan perder el tiempo porque no es su tiempo sino el tiempo de una sociedad que necesita coger

por eso nuestro grupo trabajará por un futuro de respeto tolerancia y libertad que es la opción en que estamos seguros de ello podemos reconocernos la inmensa mayoría de los vascos de su responsabilidad también depende termino lehendakari

y rechazado nuestras propuestas algunas han tenido ustedes que ponerlas después en práctica por cierto

creemos que es necesario defender el pluralismo en euskadi y los derechos de todos los vascos evitar la decadencia a la que nos conduce la obsesión por las identidades y abrir crecientes espacios de libertad en nuestra sociedad durante los últimos dieciocho meses miles de familias vascas

muchas más están sufriendo los efectos de una crisis económica y social muy grave

si nunca se justifica el debate estéril y promover el enfrentamiento en el seno de la sociedad menos aún nos podemos permitir ese lujo en momentos críticos para ganar el futuro

por aquello que nos demandan los vascos y que debería ser la prioridad de todos nosotros por una mejor sanidad de ganar la batalla a la pandemia decisiones para impulsar el empleo y la reactivación de la actividad económica de autónomos comerciantes y empresas

a nuestros jóvenes responsabilidad política desde el gobierno o desde la oposición para defender la tolerancia la convivencia entre vascos

sensatez para preservar la estabilidad de nuestro marco de autogobierno

que solo pueden concluir a la ruina y el enfrentamiento en nuestra sociedad para ese futuro y de prosperidad debemos trabajar juntos queremos dejar a nuestros hijos un país vasco mejor

y de vanguardia de españa y europa este debate debería poner las bases de tantos entendimientos como este futuro precisa nosotros nos comprometemos a trabajar por él le brindo de nuevo nuestra mano y ahora de usted depende lehendakari eskerrik asko

y llegan muchas leyes en este año dos mil veintiuno

igualdad entre otras estamos hablando de normas que son estratégicas que al mismo tiempo van a tener que por una parte que responder a las consecuencias de la crisis pandémica y además van a condicionar también el modelo social que tengamos en euskadi para las próximas décadas creemos que esta pandemia no solo nos ha traído consecuencias fatales las que todos conocemos a nivel de salud pública

un golpe traumático para nuestra sociedad en el plano económico social y también anímico y al mismo tiempo como suele suceder cuando las circunstancias son adversas hemos visto que la sociedad ha demostrado

y comunitario y en nuestro grupo estamos convencidas de que esa conciencia

de lo que nos es común y compartido y la defensa de lo público como garantía del bienestar de la ciudadanía el único de enfrentar tanto las consecuencias de la pandemia como la organización democrática de nuestra sociedad izan ere pandemiak

eztabaidagarri adieraziz el gobierno nos dice que

extraordinarias de gasto derivadas de la pandemia

pero es que además creemos que esto implica no reconocer

de la última década a esta sociedad y al conjunto de nuestro entramado institucional los servicios públicos

hasta la educación ya estaban al límite antes de la pandemia y por eso su situación hoy

difícil son precisamente los recortes de la última década los que han imposibilitado que nuestra sanidad pueda amortiguar las consecuencias de la pandemia en mejores condiciones

los que han propiciado que los servicios sociales de base estuviesen al borde del colapso solo unas pocas semanas después del inicio de la pandemia o también que las residencias de mayores hayan sido el centro

tiene que convenir conmigo el lehendakari que nuestros mayores no han sido atendidos de forma apropiada durante esta pandemia pero es que además

las residencias las trabajadoras de las residencias llevan tiempo llevan años reclamando en huelgas intermitentes mejoras para la prestación del servicio

que si se hubiera resuelto en su momento hubiera atendido mejor a las necesidades de atención de nuestros mayores estas reivindicaciones que nos hacen las trabajadoras de las residencias

solamente es que son necesarias de atender

son las que proporcionan unas condiciones de trabajo dignas y una buena calidad asistencial para las personas usuarias euskadik zentzu honetan ildo honetan

karga pribatu bat necesitamos extender la cultura de los cuidados y articular también una adecuada economía de los cuidados y digo economía porque todos estos trabajos forman parte de la riqueza

aunque aunque no se suelan reconocer el actual modelo de cuidados se ha construido sobre el ingente sobre todo trabajo de las mujeres

en ocasiones no remunerado también y lo que toca ahora es sentar las bases de un sistema vasco de cuidados público comunitario

integral integrado y universal un sistema de cuidados cuya calidad no dependa de los ingresos que tenga cada uno y que no se convierta

el negocio del que extraer beneficios económicos extraordinarios hay que poner la economía al servicio de la vida y no al revés

asunto capital que pone en jaque la existencia misma de la vida sobre este planeta es el cambio climático este año multitud de informes nos han demostrado la correlación que existe entre

de nuevas enfermedades así como el riesgo creciente también de sufrir futuras pandemias

derrumbe de zaldibar y hay que decir que este suceso se enmarca en un modelo de gestión de residuos

prima el interés de la empresa privada sobre la protección del medio ambiente y de la salud

emisiones vertidos contaminantes hablamos de las emisiones de la incineradora de zubieta fundiciones en durango vertidos a los ríos por parte de petronor otras empresas nosotras aquí

que se establecieran controles a tiempo real de las emisiones y de los vertidos de estas empresas sin embargo no

positiva el pasado ocho de septiembre también la fiscalía señaló que muchos delitos medioambientales se han archivado en euskadi por la falta de personal

varias veces hemos pedido a este gobierno que se duplique

exige la creación de zonas de exclusión para los proyectos de parques eólicos y solares debido a su impacto medioambiental

sobre este aspecto la ciudadanía alavesa está preocupada está muy preocupada por la invasión de megaplantas solares y centrales eólicas en sus pueblos y montes y ustedes

para que durante décadas seamos pagadores de facturas de luz ahora mismo en este momento no tenemos ni planes ni zonas de exclusión para los proyectos ni participación pública en la toma de decisiones difícilmente haremos una transición

ecológica de esta manera por eso nosotras apostamos por un nuevo modelo energético un modelo que apueste por la producción de energía renovable descentralizada que se gestione a través de una empresa pública que pueda enfrentarse al oligopolio energético por eso también hemos instado a crear una empresa pública a utilizar los fondos next para instalar

en zonas industriales y urbanas construir viviendas eléctricas y sin gas y favorecer el autoconsumo para librarnos de la avaricia de las empresas energéticas lehendakari hablo de la necesidad de un pacto de estado para regular el precio de la luz nosotras ese guante y tenemos además tres propuestas al menos una la empresa pública de energía que esté basada en las energías renovables dos que se intervenga en el precio de la luz y tres que es también muy importante prohibir

giratorias y esta última también es fundamental si hablamos de educación

se llama concertación casi la mitad del alumnado vasco está matriculado en colegios concertados es decir en colegios que son privados pero

del estado español es ciertamente una anomalía con respecto a europa pero es que en euskadi esta situación es todavía peor son casi veinte puntos más

en la concertada con respecto a la media del estado según los datos que el propio departamento de educación notificó hace apenas una semana la educación pública en euskadi rebasa el cincuenta por ciento de las matriculaciones en la unión europea la matriculación en la pública supera el ochenta por ciento es un dato

para la reflexión para que tomemos conciencia de la dimensión del problema que tenemos eta zergatik da hau arazo bat

nuestra apuesta decidida es por un sistema educativo público

que incluya la educación de cero a tres años porque nuestra educación pública no es solo una institución sino que es un valor

de oportunidades de niños y niñas es una fortaleza contra la segregación social y es el primer y el más importante para la socialización del euskera por eso necesitamos defender este lugar público y compartido que es la escuela pública que es donde se forma además la inteligencia la futura inteligencia y se esboza el devenir

más justa e igualitaria autogobernuari buruz para corregir todas estas deficiencias que he señalado como la relativa a la educación también

es cierto que después de cuarenta años las transferencias aún no se han completado y es cierto que ha tenido que entrar unidas podemos al gobierno de españa

de prisiones sin embargo aún estamos lejos del cumplimiento íntegro del estatuto de gernika y esto es un derecho incuestionable de la ciudadanía

pero los mecanismos de autogobierno de los que ya disponemos debemos utilizarlos correctamente por ejemplo sí querría decir que la ley de aportaciones que se nos ha presentado no cambia nada de lo fundamental y es que los municipios vascos seguirán infrafinanciados

entre los territorios históricos seguirá decidiéndose

a puerta cerrada y lejos de la soberanía que representa esta cámara

décimos que tan importante como los contenidos concretos que nos permiten desarrollar nuestro autogobierno es el proyecto político bajo el cual

nosotras no hablamos solamente del marco territorial sino del derecho democrático que tiene toda la ciudadanía a decidir sobre todos los asuntos que le competen

trasladar el centro de decisión de madrid a euskadi si este va a seguir estando siempre

federalismo errepublikanoak defenda dezakeela uste dugu defendemos un modelo de federalismo republicano que no es tan solo un modelo de organización territorial sino que es un modelo social y político donde exista un blindaje legal de lo público y del bienestar social porque tal y como demostró la crisis de dos mil ocho y nos ha ratificado esta pandemia en lo público es donde siempre se encuentran las grandes respuestas a los problemas sociales

a lo público y espera soluciones sea la salud sea la energía sea la vivienda sean las pensiones de lo que estemos hablando

el oligopolio energético los bancos la patronal los fondos de inversión la externalización en la salud la concertación en la educación no están las soluciones este gobierno

el rescate el rescate social proviene de lo público el desmantelamiento de lo público redunda en el menoscabo de las condiciones materiales de la existencia de la ciudadanía vasca para terminar

en la idea de que nosotras siempre tendremos una buena voluntad para el acuerdo lo hemos dicho por activa y por pasiva que no tenemos vértigo que no nos casamos con nadie

nuestra visión de su acción de gobierno también cuáles son nuestras prioridades y los planteamientos

no ha explicado su modelo nos ha vuelto a explicar los objetivos de su gobierno que ya los conocíamos creo que a estas alturas yo se lo he dicho muchas veces

no compartimos modelo con su gobierno pero ustedes

apelan constantemente o han apelado en ocasiones a elkarrekin podemos izquierda unida para llegar a acuerdos que vayan más allá de las fuerzas que sostienen

pero la capacidad de llegar a acuerdos en nuestra opinión no depende solo de la voluntad política creemos que nosotros hemos demostrado ya sobradamente ser capaces y tener voluntad de llegar a acuerdos con casi todos los grupos de este parlamento estén en la oposición o estén apoyando al gobierno para elkarrekin podemos izquierda unida tanto los acuerdos

o alcanzar acuerdos con ustedes no son para nosotros objetivos en sí mismos sino que dependen de las políticas que se quieran practicar por eso para nosotros es tan importante también

lo que yo he echado en falta esta mañana en su discurso si este gobierno quiere apelarnos en la búsqueda de entendimientos tiene que hacerlo planteando un cambio de rumbo en cuestiones fundamentales para nuestro grupo

en su defensa incondicional de la patronal en los conflictos con las y los trabajadores yo no voy a valorar si ustedes como ha dicho usted esta mañana han mejorado en materia de diálogo social lo que sí tengo claro es que ante cada conflicto obrero ya sea de gran empresa o sectorial su gobierno

una clara esencia antiobrera capitaneada por el departamento de desarrollo económico con el que es incompatible elkarrekin podemos izquierda unida nosotros estaremos

cuyo objetivo es que la mitad de nuestra educación esté en manos privadas subvencionadas con recursos públicos

subcontrataciones que hacen que los servicios públicos tengan peores condiciones laborales para las trabajadoras pero que son un negocio

para unos pocos estaremos enfrente por lo tanto de esa mal llamada colaboración público privada que muchas veces consiste simplemente en destinar ingentes recursos públicos a manos privadas y estaremos enfrente desde luego a una fiscalidad injusta donde la principal carga impositiva sigue recayendo sobre la clase trabajadora

low cost en cuanto a lo que usted ha denominado esta mañana el problema vasco en lo que yo creo que deberíamos tener puntos de unión creo que es posible sin embargo me ha sorprendido que esta mañana usted nos ha retrotraído a mil ochocientos cuarenta y seis

soluciones de siglo veintiuno pensamos que lo que esta mañana ha trasladado usted desde luego no parece

es cierto que se ha generado cierta expectativa incluso que algún medio de comunicación ha hablado de elkarrekin podemos izquierda unida como socio preferente del gobierno vasco

nuestra coalición se sigue situando en las antípodas de sus políticas económicas fundamentalmente y con un modelo alternativo al que no vamos a renunciar

y la reforma fiscal para la igualdad económica y para alcanzar unos servicios públicos potentes y de calidad pero muchas veces son titulares y objetivos que el amplio espectro político de esta cámara dice compartir por eso nos importa el cómo y en el cómo es donde tenemos diferencias fundamentales sobre esas prioridades y ese cómo que está recogido en nuestro programa electoral es como vamos a seguir trabajando y sobre eso es donde se va a situar la mayor cercanía o la mayor confrontación respecto a todos los grupos de esta cámara incluido el propio gobierno vasco además vamos a impulsar como ha explicado mi compañera gorrotxategi el federalismo republicano en euskadi para construir

las personas usted ha dicho esta mañana que cree que el estado necesita una reformulación es algo en lo que podríamos coincidir a mí me gustaría conocer si en esa reformulación está incluida también la monarquía no lo digo porque yo sea como usted sabe un republicano convencido lo digo porque ese sistema

la monarquía sobre estas cuestiones como le digo

socios externos de su gobierno ni tampoco una posición de postureo con las políticas que ustedes practican y que esta mañana ha explicado y donde no hemos visto ningún cambio

un socio externo de su gobierno eskerrik asko hernández jauna euskal sozialistak taldearen ordezkaria den

y la oportunidad que tiene la ciudadanía para detener los devastadores efectos del cambio climático para superar la pandemia para proteger

al más débil para extender la igualdad para generar modelos económicos de alto contenido social para atraer inversión para garantizar el futuro de los jóvenes

adquisitiva de las pensiones para apostar por la investigación que defienda el interés común para acabar con la violencia machista para proteger a todas las identidades sexuales para fortalecer el empleo estable y de calidad para afrontar sin dilación la transición energética

y solidaridad en definitiva para garantizar un modo de vida digno y suficiente para todas las personas en eso estamos los socialistas y se ha demostrado a través de las muchas medidas adoptadas en euskadi en españa y en europa estamos ante retos de gran magnitud de enorme

fue esa voluntad transformadora la que guio el programa electoral con el que los socialistas vascos nos presentamos a las pasadas elecciones autonómicas un programa en el que hicimos el ejercicio de definir los retos que tenía la sociedad vasca en las próximas décadas y trazar el camino

establecidos por la onu para dos mil treinta que fue después el que sirvió de guía para la elaboración del programa de este gobierno de coalición

esa misma mirada larga la que está concretada con objetivos y plazos en el calendario legislativo en este momento hay dieciocho proyectos de ley remitidos por el gobierno y además de cuatro proposiciones de ley impulsadas por el partido socialista en conjunto con el partido nacionalista vasco o con otros grupos parlamentarios

la ley del cambio climático la de salud pública o el estatuto de las personas consumidoras el lehendakari ha hecho un detallado repaso de los compromisos del gobierno para los próximos meses de ellos quiero destacar el objetivo común que comparten todos esos planes y proyectos en el camino de la igualdad de modernizar y reformar nuestro sistema público o de sanar las heridas dejadas por la crisis en definitiva de cumplir los tres objetivos que los socialistas nos fijamos en nuestro programa electoral y que son hoy los tres principios rectores del programa de gobierno garantizar

la economía y el empleo y no dejar a nadie atrás pero junto con ello de ir preparando euskadi para ese futuro que cada día está más cerca que es más inminente y que debe pivotar sobre cuestiones mencionadas hace un momento como la igualdad entre hombres y mujeres la emergencia climática

o la diversidad ciudadana comenzamos un nuevo curso político en una situación completamente inédita de la mayor crisis del último siglo la mayor y la más grave por su imprevisibilidad su letalidad y su efecto global han sido unos meses terribles con mayor o menor efecto todos los aquí presentes hemos sufrido de cerca

y nunca nos habíamos enfrentado a algo similar hoy podemos decir con orgullo que en euskadi hemos estado a la altura que en nuestro sistema de salud con el personal sanitario a la cabeza ha respondido con profesionalidad y entereza a una lucha durísima por la escasez

y por el desconocimiento global en la forma de propagación del virus que ha respondido la ciudadanía mayoritariamente comprometida con el cumplimiento de las medidas preventivas y el llamamiento a vacunarse y no tenía por qué ser así porque ahí tenemos los movimientos de contestación surgidos por ejemplo en países como francia como italia o alemania

el bosque de unas sociedades la vasca y la española que han actuado con responsabilidad y con solidaridad sobre todo esto porque cumplir las normas

de solidaridad con los más vulnerables que nos están permitiendo avanzar a pasos agigantados en el ritmo de vacunación y esperemos en la pronta recuperación de esta pandemia con aciertos y con errores por supuesto nadie puede pretender hacer un balance triunfalista

hoy podemos sentirnos orgullosos de un autogobierno vasco que ha demostrado toda su fortaleza y capacidad de acción cuanta más falta hacía

que tiene que recuperar ya la presencialidad en la atención primaria lo ha hecho el sistema educativo y todos nuestros profesores y profesoras también en una situación complicadísima y lo han hecho

los niños y las niñas nuestros hijos y nuestras hijas que han dado un ejemplo a esta sociedad por su disciplina y por su capacidad de comprender una situación de semejante complicidad y magnitud lo han hecho todos y cada uno de los departamentos ofreciendo soluciones para el empleo el sector del turismo y el pequeño comercio duramente y especialmente golpeados pero que han encontrado en el gobierno y muy especialmente en el consejero javier hurtado un aliado sensible y defensor de sus demandas

de transporte los servicios sociales un buen funcionamiento de las instituciones al que también por supuesto ha contribuido el gobierno de pedro sánchez y un modelo de cogobernanza ejemplo de respeto a nuestro modelo institucional y político y el mejor ejemplo lo tenemos como decía

hoy tenemos nada menos que al noventa por ciento de la población vasca vacunada con al menos una dosis y más del ochenta y cinco por ciento con la pauta completa y esa es de todos los datos que vamos a escuchar hoy la demostración más palpable de que estamos venciendo al virus y que estamos controlando en sus peores efectos y en la recuperación de la normalidad y este éxito solo podemos entenderlo si aceptamos que el mérito no es individual que el mérito es compartido

es porque la colaboración está funcionando es porque lo está haciendo bien el gobierno de pedro sánchez y también las comunidades autónomas

un esfuerzo del que solo se ha ausentado en la política nacional el partido popular

en el cuanto peor mejor en la crítica obstruccionista y el bloqueo también lo es porque la ciudadanía está respondiendo porque los medios de comunicación están contribuyendo a ello sintámonos orgullosos de este logro que es un logro de país porque la realidad demuestra

hay otra forma de entender la convivencia en sociedades democráticas y en nuestro sistema autonómico también que es más eficaz cuando apuesta por la unidad de acción por la lealtad mutua y las herramientas federales solo el año pasado se celebraron más de doscientos conferencias y comisiones sectoriales con todas las autonomías en lo que llevamos de dos mil veintiuno cerca de ciento veinte y hay que sumar a ello las conferencias de presidentes que aunque parezca que desde euskadi siempre tenemos que ir un poco a rastras

y en algo tendrá que ver que los socialistas estemos en el gobierno algo tendrá que ver que hoy gobierne españa un partido que cree en la pluralidad del país y en la colaboración mutua en los siete años de gobiernos del partido popular se convocaron solo dos

en año y medio ningún gobierno ninguno ha demostrado mayor compromiso por la colaboración mutua ningún gobierno ha demostrado mayor compromiso con el cumplimiento del estatuto como está ocurriendo con el traspaso de transferencias pese a las dificultades añadidas de la pandemia entre ellas la de prisiones

ya gestionaba de forma conjunta a esta materia desde hace diez años gracias al acuerdo de la entonces consejera y hoy vicelehendakari idoia mendia

coordinada en materia sanitaria educativa de orientación laboral y de gestión de penas de régimen abierto porque es con los socialistas como siempre y no porque los señores de podemos estén en el gobierno cuando avanza el estatuto y eso lo saben absolutamente todos ustedes

podremos coincidir en las dificultades para negociar algunas transferencias podremos hablar del afán recentralizador que ha movido al gobierno de españa cuando ha estado en manos del partido popular

que ha habido por momentos en torno a nuestro autogobierno y ahí por supuesto siempre nos van a encontrar a los socialistas

es que para justificar algunas iniciativas en los próximos meses se recurra a presentaciones de libros con más carga ideológica que jurídica cogobernanza pues hacia arriba con europa ni la distribución de vacunas ni la puesta en marcha de los fondos next generation serían posibles fuera de ese

y cogobernanza también hacia abajo porque también aquí en euskadi hemos descubierto la necesidad de hacer cierta gimnasia federal para el trabajo común con diputaciones y ayuntamientos

y a partir de ahora qué hemos pasado la fase de lucha contra el virus este primer año de legislatura ha sido el de la resistencia señorías ahora nos toca la de la transformación bidea markatuta dago ibilbide orria ezaguna daukagu

se ha hecho mucho y buen trabajo pero ahora toca poner en marcha las bases de esa transformación una transformación del modelo sanitario

de esta pandemia ha sido haber puesto encima de la mesa de forma extremadamente cruda también

y la importancia de reconocer social y económicamente a un sector cuyas tareas han recaído tradicionalmente sobre las mujeres en el ámbito familiar o en el mejor de los casos

y esto no puede seguir así por justicia social pero también porque resulta a todas luces insostenible en un contexto

de cambios en los modelos de familia de mayor movilidad y flexibilidad laboral

sino por dar una vuelta completa a nuestro sistema de servicios sociales para facilitar la autonomía y el empoderamiento de las personas fue este uno de los ejes de nuestra campaña electoral y que tuvo un efecto directo en el decreto de estructura de este gobierno con la creación de atención sociosanitaria dependiente del departamento de salud y que nace con la vocación de coordinar la atención de todas las personas especialmente vulnerables mayores jóvenes niñas niños personas con discapacidad y esto implica también tener una visión global que afecta al departamento de salud por supuesto pero también al de igualdad

y políticas sociales al de trabajo y empleo a las tres diputaciones y a los ayuntamientos

idoia mendia a la cabeza ya está avanzando en esta línea con programas novedosos en lanbide para formar perfiles en nuevos nichos de empleo que requieren de personal cualificado como el de los cuidados pero hace falta ir mucho más allá los socialistas seguimos apostando por la implantación de un modelo comunitario que ya está contemplado en la ley doce barra dos mil ocho de servicios sociales y por la constitución

desde la que rediseñar el esquema de provisión de cuidados desde la infancia

un nuevo modelo de cuidados desfamiliarizado y desfeminizado liderado por el sector público y garantice que todas las personas en situación de dependencia que deseen seguir viviendo en sus domicilios puedan hacerlo

tenemos que afrontar también la transformación en lo económico y en lo laboral señala la economista mariana mazzucato que cuando el gobierno carece de una teoría clara de lo que debería hacer

se vuelve lento y adopta generalmente el papel equivocado en euskadi tenemos una misión clara

este es uno de los diez objetivos de país con el que nos hemos comprometido los socialistas y de ahí nuestra certeza en poder conseguirlo implicándonos también en el desarrollo de la capacidad de nuestro tejido empresarial los socialistas con nuestra participación en el gobierno de españa y también en el gobierno vasco estamos ejerciendo una labor de mediación

importante por supuesto que sí contando con los ayuntamientos que tanto han padecido el cierre de empresas tractoras en sus localidades y comarcas y estoy pensando por ejemplo

para la reactivación económica y el empleo es la guía donde se asienta la recuperación de la crisis sufrida este último año y medio al estar en plena sintonía permanente con las medidas que se están adoptando desde la unión europea y desde el gobierno de españa

oportunidad para la recuperación y la transformación de nuestra economía en el camino de la sostenibilidad la descarbonización también de la digitalización para subirnos al tren de esa cuarta revolución industrial que todavía tenemos pendiente aquí en euskadi unos fondos que son realidad en buena parte gracias a un gobierno socialista que ha estado a la cabeza de su impulso a nivel europeo

esta cámara ha dedicado ya un pleno monográfico a debatir estos asuntos y además de largas sesiones en comisiones y estoy seguro que de aquí en adelante muy probablemente tendremos alguna más está también toda la batería de medidas sociales y económicas que está impulsando el gobierno de españa desde las prestaciones para los erte que han sido fundamentales para la supervivencia de tantas empresas

ha sido posible por fin el acuerdo en torno a la ley de aportaciones que regula la distribución de los recursos derivados del concierto económico un instrumento fundamental

pero en este campo también tenemos deberes por hacer por supuesto como saben

el lehendakari de situar la cifra del paro por debajo del diez por ciento en toda la legislatura pero por un lado está el reto cuantitativo y por otro el cualitativo porque además de generar puestos de trabajo tenemos que conseguir que estos sean estables de calidad inclusivos e igualitarios y en ello está el departamento de trabajo y empleo

una estrategia vasca de empleo con mirada a dentro de diez años está la reforma de lanbide para hacerla realmente eficaz en la cualificación y colocación de las personas

renta de garantía de ingresos una herramienta desde luego fundamental para profundizar en la cohesión social de euskadi y conseguir que nadie se quede atrás están ya listas las bases de una ley

y no tenemos que remontarnos mucho para comprobar que hablamos de realidades tangibles y objetivas como lo son los acuerdos alcanzados en la mesa de diálogo social la tercera prórroga de los complementos de los erte para los salarios más bajos

con programas de formación y recualificación y cobertura social para los trabajadores afectados realidades como son el acuerdo sobre nuevos nichos de oportunidades de empleo el que persigue ampliar las cualificaciones la formación profesional para facilitar la adaptación de la formación de las necesidades reales de la empresa

tenemos que afrontar también la transformación medioambiental porque el reto de la pandemia no puede desviar el foco de la emergencia climática que ya viene de antes y que sigue igual de presente el gobierno cuenta ya desde la legislatura pasada cuando esta área la gestionaba el consejero arriola con un ingente trabajo del que destacan tres proyectos de ley

me refiero a la ley de conservación de patrimonio natural a la ley de administración ambiental que viene a reordenar y actualizar el marco legislativo actual y por supuesto

una ley integral con objetivos de reducción de emisiones y obligaciones tanto para las empresas como para las administraciones un proyecto ambicioso alineado

entre los agentes privados y públicos una labor que ya se inició en el periodo

los socialistas vascos creemos que euskadi puede liderar ese global y convertirlo también en una palanca de transformación hacia una economía más competitiva y climáticamente neutra queremos situar la cuestión climática como un objetivo central de país y para ello el desarrollo sostenible debe atravesar

hablar de movilidad tenemos pendiente la ley de movilidad sostenible implica hablar de economía circular

cosas muy interesantes en este campo lo están haciendo nuestras empresas lo está haciendo la administración por ejemplo la diputación de gipuzkoa con el liderazgo de los socialistas también por supuesto lo está haciendo el gobierno vasco a través del basque circular hub para formar jóvenes profesionales especialistas en economía circular o el plan

y bioeconomía dos mil veintiuno dos mil veinticuatro implica hablar de nuevos modelos de urbanismo porque esa euskal hiria que aspiramos

atendiendo a criterios de habitabilidad de eficiencia energética de movilidad sostenible también de calidad de empleo introduciendo las tecnologías y un reparto de espacios que faciliten la convivencia o el

debemos apostar sin duda por los servicios públicos mejorarlos dotarlos de herramientas y presupuestos para afrontar con mayor garantía unos retos de futuro que ya tocan a nuestra puerta en euskadi la recaudación va por términos positivos los nuevos fondos europeos

en los próximos presupuestos unos presupuestos con carácter inversor expansivos transformadores progresistas

avanzamos hacia un dos mil veintidós con un mayor gasto público probablemente el mayor de la historia siempre en beneficio de la mayoría unos presupuestos que cuentan ya

con el respaldo de la mayoría que conformamos los dos grupos que sustentamos al gobierno de coalición lan asko dugu aurretik etxe honetan

aitzakia izan behar señorías me gustaría dirigirme a las formaciones nacionalistas

si quieren volver sobre lo mismo ya conocen el procedimiento pero también

una nueva ponencia puede volver a constituirse como establece el reglamento de la cámara

lo estima necesario con un objetivo y un plan de trabajo esa posibilidad está en manos de los grupos como lo está también presentar un texto articulado que se someta a votación miren en esta cámara se puede llegar a acordar un texto político que puede contar con una mayoría

para conseguir la independencia pero sean conscientes que si lo hacen estarán fracturando la convivencia el pluralismo de una sociedad que se verá aislada y estancada social y económicamente y no

y constituyó un rotundo fracaso en esta cámara todos sabemos que una reforma del estatuto no abrirá el camino a la independencia los retos que tenemos como sociedad son imposibles de abordar desde la fragmentación

los retos de la política actual generan espacios diferentes para decidir para compartir y también para gestionar todos ellos están relacionados y todos marcan la necesidad de colaboración el estatus político

y funciona tiene su expresión vasca su expresión española y su expresión europea facilita el protagonismo y la acción de todas las corrientes políticas su representatividad

esta realidad de gobernanza plural que tenemos en euskadi nuestra referencia nunca va a ser

nuestra referencia siempre será el siglo veintiuno a nosotros a euskadi se le espera en eso en la contribución desde lo autonómico a lo local y a lo global

euskadi puede estar por construir pero no por descubrir porque hace mucho tiempo que sabemos lo que somos euskadi necesita seguir construyendo convivencia una convivencia en la que no quepa la violencia de ningún tipo y hacia ningún colectivo una convivencia en la que no haya

en la que no se exalte a quien practicó el terrorismo en cualquiera de sus expresiones fueran del tipo que fueran tuvieran los nombres que tuvieran se llamaran como se llamaran y en la que se avance en la memoria en la justicia y en la reparación

es inadmisible cualquier acto de homenaje público a los restos de eta

a quienes asesinaron a centenares de ciudadanos y extorsionaron a miles de personas en este país

se han convertido en un instrumento de humillación a las víctimas mediante un sucedáneo de glorificación

y acabar con esas prácticas tan humillantes tan aberrantes

y lo saben lo saben de sobra precisamente ahora cuando se cumple el décimo aniversario del fin de eta y que esta sociedad debería conmemorar como se merece es un buen

rompan amarras con ese pasado que les persigue y nos acompañen al resto de fuerzas políticas en la construcción de una euskadi más justa y más decente

única y exclusivamente depende de ustedes tampoco me quiero olvidar de todos esos episodios de violencia que hemos vivido durante los últimos meses

agresiones ideológicas asesinatos de mujeres a manos de sus parejas

contra esos comportamientos que en ningún caso caben en nuestros días pero tan contundentes como con esos casos lo debemos ser contra aquellos que promueven y los alientan a través de sus discursos de hoy

se convierten en cómplices amaitzen noa porque como decía son muchos los desafíos que tenemos como país y su consecución depende del concierto de absolutamente todo de partidos políticos

de los profesionales públicos y del conjunto de la sociedad un espacio para el acuerdo que deberá ser sincero para ser realista que deberá caminar hacia el encuentro con propuestas razonables con puntos intermedios entre las aspiraciones partidarias de cada uno de nosotros

el entendimiento múltiple entre diferentes es bueno para la ciudadanía

pero sobre todo también para la propia política y subrayar las diferencias no debe impedir recorrer etapas juntos lo peor de esta crisis ya ha pasado hemos superado el tiempo de la resistencia y estamos ya en el de la reactivación y la esperanza los socialistas llevamos tiempo practicando una política de acuerdos

ha permitido al país resistir a la mayor crisis económica sanitaria y social que podíamos prever ahora deben ser esos mismos acuerdos los que nos permitan

en este país y esta cámara tiene que estar a la altura del momento para hacer frente al reto económico para hacer frente al reto climático

al reto social porque es esa la lucha contra la desigualdad la que mueve todas las demás cuestiones y sobre la que debe de pivotar toda la agenda política del país

esta sí es la verdadera tarea inacabada que tenemos en euskadi a ese desafío invitamos a todos los grupos de esta cámara eskerrik asko eskerrik asko

prekarizazioari aurre egiteko proposamenik ez duzue ekarri formular cualquier objetivo en materia de empleo para este país que no sea avanzar hacia el pleno empleo de calidad

y más en un gigantesco escenario de relevo de mercado laboral con el masivo proceso de jubilaciones que se dará

usted hoy nos ha planteado la reintegración foral plena

ustedes saben que ha llegado el momento de avanzar y de entrar en una fase resolutiva ha llegado la hora de decir la verdad si creemos en la democracia y en las decisiones que tome este pueblo o no creemos

de respetar la voluntad mayoritaria de este pueblo de que todas y todos podamos defender y también materializar

democráticos si tienen el respaldo de la mayoría batzuk badute aukera hori beste batzuk ez daukagu ez daukagu eta

una transformación energética radical para abandonar los combustibles fósiles para

un trastorno climático fuera de control ataka historiko baten aurrean gaude

mehatxatzen duen errealitate demografiko honen aurrean premiazkoa iruditzen zaigu todo ello requiere un profundo sentido comunitario sentido de pertenencia a una comunidad abierta y solidaria y en una época de desarraigo y crisis identitaria en

la de pertenencia toda propuesta transformadora ha de estar engarzada con las creencias o la memoria más enraizada en el imaginario nacional y nos vale aquí el concepto de nación

o sea ha hablado tan claro que nos ha dicho que su propuesta es que la mayoría se someta a la minoría

del partido socialista obrero español mejorar el estatuto sí cambiar el estatus no y precisamente se trata de eso

para que se cumpla el estatuto el vigente no cumplido y el futuro estatutu berritu hobetu bai

por qué ha llegado a un acuerdo con el pnv eta esaten du ja elkarrekin podemos

ha sido un movimiento extraño el partido socialista

el partido socialista está maniatado y muchas veces amordazado

estoy convencida de ello espero que sea más pronto que tarde

ya sobre el estatus porque el movimiento extraño y que están maniatados y amordazados ya se ha dicho la conclusión es que se puede hablar o se puede acordar con cualquiera menos con el pnv y no es porque quiera

sino porque quieren preparar la alternativa otra cosa es que se den las condiciones como

el debate sobre el derecho a decidir no es un obstáculo insalvable para entenderse con el partido socialista no tiene por qué

cuando hagamos un acuerdo se podrá ver qué cosas quedan dentro del acuerdo y qué cosas quedan fuera

que cada uno tenga las manos libres en algunos temas y en otros tengamos un acuerdo de gobierno desde un punto de vista de izquierda y progresista luego bienvenidos al club

el asunto es dónde queda el objetivo estratégico si es el de la construcción nacional o es el de la denominada

une baten aurrean gaude el momento es diferente si bien en este debate se han producido los esquemas habituales como no puede ser de otra manera la oposición subraya las diferencias y carencias de la gestión dibuja una fotografía mayoritariamente en negativo que

a mi entender quizás hasta excesivamente dramática en algunas intervenciones

he contrastado esta fotografía con una visión más positiva una visión que pone en valor el esfuerzo realizado por el conjunto de la sociedad vasca y los resultados obtenidos

no he ocultado las sombras esta mañana he reconocido los errores que hayamos podido

pero también diré que la propia organización de naciones unidas la propia onu ha reconocido el fracaso colectivo en la gestión de una pandemia

he reconocido el sufrimiento de las personas y de los colectivos más desfavorecidos también los problemas de empresas pequeños negocios o personas autónomas o la precariedad del empleo he dado a conocer la actuación integral

en el cumplimiento de los compromisos adquiridos hace un año de eso se trata de haber presentado un programa de gobierno y dar cuenta rendir cuenta aquí de lo realizado durante un año en orden a ese cumplimiento del programa de gobierno

muy especialmente sanitarios y sociosanitarios muy especialmente hoy nos encontramos en un momento de puente entre dos tiempos un momento de transformación global que mira a la próxima década

la mano a la colaboración reitero la disposición abierta a dialogar y negociar en torno a la propuesta de presupuestos del próximo año dos mil veintidós que va a marcar el inicio de un nuevo ciclo

este compromiso con el diálogo y la colaboración es compartido en el seno del gobierno también entre los dos grupos que lo sustentan entre el partido nacionalista vasco y el partido socialista de euskadi y agradezco la labor desarrollada por ambos grupos parlamentarios

condicionado por la pandemia ha sido una dura travesía en la que siempre hemos encontrado comprensión

una cercanía política institucional y también personal emocional que agradecemos especialmente en momentos de gran afección en todos los órdenes de nuestra vida en comunidad

quiero proceder a una valoración de la respuesta a la pandemia según lo que han sido algunas de las intervenciones primeras en la sesión de la tarde

considero imprescindible realizar una valoración en su justa medida de la respuesta ofrecida a la pandemia

por parte de la sociedad que de forma mayoritaria ha atendido ha comprendido y ha cumplido las directrices que han afectado a nuestra vida personal familiar y social lo he dicho y lo reitero no señora iriarte enfado no

seriedad rigor y exigencia de autorresponsabilidad es lo que he venido subrayando una y otra vez en primera persona del singular y en primera persona del plural no en segunda persona ni en tercera persona

podemos afirmar con orgullo que la respuesta de la sociedad vasca ha sido ejemplar y lo he dicho en otras ocasiones también

y quiero compartir una valoración objetiva y comparada objetiva y comparada en el ámbito de la prevención este año dos mil veintiuno en euskadi se han realizado cien mil trescientos pruebas por cada cien mil habitantes

y la fuente es el ministerio de sanidad en el ámbito de hospitalizaciones de personas enfermas las hospitalizaciones desde el inicio de la pandemia han sido ochocientos doce por cien mil habitantes en euskadi

han superado las ochocientos ochenta como media en el ámbito de asistencia a las personas más graves los ingresos en uci desde el inicio de la pandemia han sido setenta y tres por cien mil habitantes en euskadi en españa

y la fuente sigue siendo el ministerio de sanidad completo la evaluación con el resultado fundamental de todo nuestro esfuerzo esto es

el incremento de personas fallecidas en dos mil veinte en relación al anterior fue del doce coma cuatro por ciento en euskadi en españa fue

y el máximo se produjo en madrid con el cuarenta y uno coma dos por ciento y la fuente es el instituto nacional de estadística

una evaluación objetiva en euskadi se han realizado más test ha habido menos personas hospitalizadas y menos ingresadas en las uci

en euskadi han fallecido comparativamente menos personas que en la media del estado no voy a entrar en lo que es referencias a las situaciones que se han vivido en otras comunidades del estado podríamos haberlo hecho mejor sin duda sí

pero reconozcamos también que lo hemos hecho mejor que nuestro entorno

sigue avanzando en la recuperación de la atención presencial de hecho la propuesta

se orienta a favorecer el retorno al desempeño presencial en la administración pública y las empresas esto significa retomar de forma gradual los servicios de atención primaria hospitalaria de consulta médica

y simplemente quiero decir lo que esta mañana he subrayado la estrategia sociosanitaria el acuerdo alcanzado también el pasado veintitrés de agosto

niveles institucionales diversos y en el que la competencia sobre lo que puedan ser algunas de las cuestiones que se han planteado corresponden a las diputaciones

en relación a las propuestas de eh bildu en el área económica y el empleo cuáles podrían ser los puntos de trabajo

cuáles eran los temas solicitados en marcha le planteé también en el área de servicios públicos esenciales cuáles eran los puntos de trabajo en común

solicitados que estaban en marcha en el ámbito de gobernanza y autogobierno también le planteé los puntos de trabajo en común y

así como también los temas solicitados que ya estaban en marcha señoras y señores de eh bildu todo sería mucho más fácil si fueran coherentes con ustedes mismos y con la sociedad lo cierto es que les resulta

mucho más fácil pactar en españa o en navarra que aquí eso sí

no ya solo por lo que puedan ser estrategias o tácticas a futuro sino porque el gobierno de navarra les necesita y porque el gobierno español en alguna medida también les necesita nosotros contamos con mayoría absoluta

y aun así tenemos voluntad de llegar a acuerdos esta semana por ejemplo han aprobado ustedes el techo de gasto del gobierno español supuestamente a cambio de nada yo no entiendo que muestren más confianza al presupuesto español que al presupuesto vasco por ejemplo en dos ejercicios anteriores como se ha manifestado elkarrekin podemos estamos trabajando en la mayor parte de las materias que ustedes denominaron el escudo social vasco en su propuesta

casi tres de cada cuatro de sus propuestas están en marcha la excepción principal son las que sobrepasan nuestro ámbito competencial que son

las políticas públicas que se aplican en euskadi las políticas públicas y también las políticas público privadas

son un referente para otros ámbitos del estado y de las autonomías en las que cogobiernan lo mismo ocurre por ejemplo con la agenda dos mil treinta así nos lo han confirmado tanto el señor pablo iglesias cuando vino aquí a euskadi como también la propia ministra y coordinadora general

ojalá podamos avanzar en nuevos acuerdos como los que hemos alcanzado hasta la fecha el gobierno y los grupos parlamentarios

compartimos la voluntad de dialogar y negociar con todos los partidos de la oposición también con el popular ciudadanos a pesar de que no tuviéramos ninguna propuesta en concreto eso sí con la debida dosis de realismo seriedad y discreción

merece nuestra disposición es total lo era cuando no teníamos mayoría absoluta obviamente y lo es ahora que la tenemos

el pasado curso se han aprobado ciento trece asuntos en el pleno de este parlamento ciento trece en prácticamente la mitad un cuarenta y siete por ciento se han negociado y acordado el apoyo de otros grupos parlamentarios

obvio que hay que contar con quien refleja la mayoría absoluta pues bien el cuarenta y siete por ciento de las iniciativas que han

del beneplácito para ser aprobadas se han negociado y acordado con el apoyo de otros grupos parlamentarios además de los grupos que sustentan al gobierno vasco

vamos a trabajar para acordar los presupuestos del año dos mil veintidós porque van a marcar el punto de arranque del relanzamiento económico y social de euskadi

merece aunar todas las fuerzas posibles entrando a algunas cuestiones propias de las intervenciones de cada uno de los grupos parlamentarios

porque diversos grupos parlamentarios han hecho referencia a los mismos temas pero entrando en las cuestiones concretas

mire yo no tengo ningún problema en denominarle vox ninguno en absoluto

reglamento de la cámara dice en cuanto a lo que es la conformación de los grupos parlamentarios usted es grupo mixto vox

y en todas las intervenciones hago referencia al grupo mixto vox y en todo caso

usted misma se puso el cordón sanitario cuando rechazó reunirse conmigo en la segunda ronda de reuniones con los líderes o con los portavoces de los grupos parlamentarios yo le convoqué como lo hice en la primera ronda

primero este tipo de actos son recurridos tanto al tribunal superior de justicia del país vasco como a la audiencia nacional

como no lo ha sido el convocado para este próximo sábado hoy mismo por la audiencia nacional segundo el criterio del gobierno vasco es claro rechazo a cualquier forma de enaltecimiento del terrorismo o la violencia rechazo a las actitudes que puedan herir la sensibilidad de las víctimas o revictimizarlas el gobierno vasco va a participar mañana en el acto organizado por el centro memorial de víctimas del terrorismo tercero

el presente y el futuro deseado necesita aportaciones constructivas no alimentar la crispación creo que eso es el pasado indeseado ya

por lo demás usted ha subido a repetir sus lugares comunes creo que podría calificarlas también como exageraciones y populismos

y a continuación nos señala que su proyecto para euskadi es más españa y menos autogobierno en realidad viene a imponer el modelo español

señor iturgaiz con respecto a alguna de las cuestiones concretas que usted ha mencionado respecto a los ataques a militantes de su partido

por la mención que usted ha hecho de que yo no he dicho nada en la intervención de esta mañana es verdad no he hecho ninguna a esta cuestión en la intervención de esta mañana pero le he escrito a usted personalmente en tantas ocasiones como hayan sido estas situaciones absolutamente despreciables

lo he criticado en público y le reitero hoy y lo diré tantas veces como haga falta

ambulancias municipales rastreadores repunte estacional de paro luego haré referencia a algunas de las cuestiones señor iturgaiz y frente a sus datos estacionales creo que euskadi es hoy la comunidad con menos paro de españa en todo caso autocomplacencia

un riesgo que pudiera afectar solo al gobierno se nos acusa permanentemente en todo tipo de debates de política general o de debates de investidura en su caso también de autocomplacencia y creo que no es un riesgo insisto que pudiera afectar solo al gobierno también a un discurso como el suyo por ejemplo autocomplacencia es criticarlo todo criticarlo todo y no comprometerse en nada a pesar de insistir en lo que es un discurso de mano tendida

frente a la demagogia yo le he ofrecido autocrítica creo que toda una primera parte de la intervención de esta mañana

lo ha sido en euskera eso sí le he ofrecido datos objetivos y he ofrecido

usted habla de negacionismo y también hay negacionismo del progreso de esta sociedad a pesar de las dificultades u obstáculos negacionismo de la gravedad de la crisis sobrevenida de la pandemia

la mitad de su discurso ha sido para criticar al gobierno de coalición de sánchez y el apoyo del partido nacionalista vasco al gobierno de coalición de sánchez

quinientos kilómetros más al sur esto es el parlamento vasco me referiré luego a educación pero también le recuerdo por una mención que usted ha hecho que tenemos una de las mejores formaciones profesionales del mundo y tenemos el más porcentaje el más alto porcentaje de titulados

y creo que eso mismo en sí mismo habla muy bien de la educación vasca en su conjunto también de la primaria y de la secundaria dice que tenemos

simplemente dígame usted se lo he planteado en algún otro pleno de control al gobierno dígame usted si está de acuerdo en cumplirlo en su totalidad en su totalidad

y esta no es una cuestión de obsesión identitaria sino de cumplimiento de la legalidad espero que demostrar esa voluntad con hechos según lo que puedan ser más marcos de colaboración y la responsabilidad de la que tanto ha hablado en su

al sistema educativo y el euskera según lo que usted ha dicho ha hecho referencia al pretendido fracaso del sistema educativo vinculando también al euskera primero

crece año a año y supera el ochenta y uno por ciento segundo un setenta y uno por ciento de las y de los jóvenes entre dieciséis y veinticuatro años saben euskera es el triple que hace treinta años tercero el indicador

clave de calidad del sistema educativo es la tasa de abandono temprano en euskadi insisto es del seis coma cinco por ciento la media europea es del diez por ciento

cuarto desde hace tres años más de la mitad de las y de los alumnos

es del cincuenta y tres por ciento crece año a año y hablo de la universidad pública quinto

con sesenta y nueve tesis treinta y cuatro de ellas internacionales

hezkuntza hitzarmena que dé una respuesta global

tanto en el dominio de las dos lenguas oficiales como en los resultados académicos el euskera es también una lengua de comunicación por tanto

al ámbito social al ámbito cultural o al ámbito del ocio este es un reto que supera a las aulas y que implica el compromiso individual y social

esta mañana he puesto el acento en el consenso logrado con la ley del euskera hace casi cuarenta años y ahora se trata de reforzar

he extraído o me ha parecido que tiene contenidos contradictorios por una parte agradezco su tono positivo y su expresión de voluntad de acuerdo por otra parte lamento en sus críticas el recurso a los tópicos como el de los recortes en los servicios públicos y de austericidio

no puedo compartir con usted esta apreciación y a las pruebas me remito en los últimos cinco años el presupuesto en educación ha pasado de dos mil seiscientos sesenta y cinco millónes en dos mil diecisiete a dos mil novecientos ochenta y tres millónes

a dos mil novecientos ochenta y siete dos mil novecientos ochenta y tres

en el mismo periodo del presupuesto de salud ha pasado de tres mil quinientos cuarenta y dos a cuatro mil ciento ochenta millónes

me quiero quedar con lo primero el acuerdo y la colaboración que es lo que necesita esta sociedad energiaren inguruan gero ere aipatuko dut

pero creo que forma parte del grupo elkarrekin podemos del mismo grupo a pesar de que su mismo grupo tenga dos intervenciones

una a la otra en todo caso al señor hernández le diría que creo haber respondido esta mañana a todo lo que me planteaba esta tarde nuestro modelo es el modelo de desarrollo humano sostenible y la agenda dos mil treinta

nuestra prioridad son los servicios públicos esenciales los servicios públicos sociales

educación salud protección social nuestro modelo de autogobierno mira al futuro precisamente porque está enraizado en la historia de eso hablaré también posteriormente y recuerdo también que el modelo que se critica nos ha llevado a tener el paro más bajo del estado la renta

marcos que engloban determinadas intervenciones de los grupos parlamentarios euskadi ha perdido empresas empresas en crisis pérdida de arraigo

de que se han cerrado empresas y negocios durante la crisis sobre todo en el sector servicios y especialmente en la hostelería el comercio y el turismo

un cuarenta por ciento corresponden a la hostelería y un treinta por ciento al comercio el proceso de recuperación paulatino de la normalidad va a permitir reactivar la vida social y económica plena de hecho mañana en el consejo asesor del labi según el dictamen que

las recomendaciones de la comisión científica técnica reunida hoy y creo que hay que subrayar que euskadi es un país atractivo y frente a determinadas objeciones a la realidad

las siguientes noticias laguardia albergará el mayor centro de inteligencia artificial de europa talgo y repsol dan un paso firme para poner en marcha el tren de hidrógeno macron respalda la apuesta de la empresa vasca caf en el mercado francés

de sestao para ponerla a plena producción empresas de euskadi trabajan en el desarrollo tecnológico de la movilidad eléctrica a través de la iniciativa basque volt

en cinco plantas de hidrógeno la empresa finlandesa iqm líder europeo en computadoras cuánticas se instala en euskadi

repsol traslada a euskadi las sedes de la división industrial y la división de clientes la empresa finlandesa vuelo inicia

los ensayos de un prototipo de plataforma para aprovechar la energía de las olas

compra la americana azr y se convierte en líder mundial del sector del reciclaje de residuos de acería faes farma continúa su expansión y compra una firma en guatemala por veinticinco millónes de euros euskadi sienta las bases de su nueva industria del hidrógeno con mil trescientos millónes de inversión google

esto es también el día a día de la economía vasca inversión expansión alianzas competitividad y generación de riqueza y empleo desde el gobierno apostamos por participar en empresas tractoras y punteras a través del fondo finkatuz esta mañana he hablado de la sociedad creada

que estamos dispuestos a ampliar hasta trescientos para favorecer el arraigo de las empresas vascas creo que hay ventajas competitivas de euskadi no porque lo digamos nosotros que también sino porque lo dice también el instituto vasco de competitividad

alto nivel de cualificación en educación terciaria ocupamos el puesto veintitrés sobre doscientos dieciocho regiones de europa alta productividad superior a la media de europa y similar a alemania entramado científico tecnológico

innovación empresarial base de proveedores sólida y de calidad posicionamiento líder en europa en digitalización estrategia ris tres avanzada y

elevado nivel de internacionalización el treinta por ciento de empresas exportadoras regulares administraciones públicas profesionales apoyando al desarrollo económico social equilibrado alto nivel de autonomía incluida la fiscal y con capacidad de desarrollar políticas industriales de innovación educativas y sanitarias propias

líder en españa y veintiséis en el puesto de doscientos dieciocho regiones en europa

altos niveles de inclusión y equilibrio social somos líder en españa y el treinta de doscientos dieciocho regiones en europa euskadi es un país competitivo

y la actividad económica digitalización innovación han sido también menciones también por parte de eh bildu somos

del nueve por ciento y el que viene y los siguientes será del seis por ciento como mínimo euskadi esa euskadi que según lo que nuestro planteamiento señor iturgaiz parece que queremos que salga de europa euskadi ha sido calificada por la comisión europea como polo de excelencia europeo en materia de innovación

referencia por lo tanto a la inactividad del gobierno para la recuperación económica todos nuestros programas de ayuda a la empresa y la industria han sido reforzados

y presentándose en masa a estos programas hay necesidad y hay capacidad para retomar las inversiones y los proyectos de futuro el resultado de estos programas es claro la industria vasca ha salido con fuerza de la crisis volvemos a exportar

y por cierto señora martínez en relación a la hostelería el comercio y el turismo

especialmente golpeado por las restricciones restricciones por cierto similares cuando no menos que de otras comunidades

nuestro apoyo ha sido constante hemos puesto en marcha medidas y ayudas directas dirigidas al sector por importe de ciento veintiuno millónes de euros

dirigida a los locales de ocio nocturno se aprobó el martes siete con un importe de doce coma seis millónes en el ámbito de la energía y el medio ambiente hemos aprobado la ley de sostenibilidad energética de las administraciones públicas la ley de administración ambiental

y coincido en la necesidad de actuar urgentemente recuerdo que aprobamos la declaración de emergencia climática en dos mil diecinueve cuando algunos todavía caricaturizaban

fuimos un gobierno pionero vamos a acelerar el proyecto de ley de transición energética y cambio climático que remitiremos a este parlamento este proyecto será una palanca fundamental para impulsar la transición energética las energías renovables y la lucha contra el cambio climático esta es una prioridad dos de los diez objetivos de país para esta legislatura son aumentar las energías renovables y reducir las emisiones

egoera ahulenean dauden pertsonei energiaren fakturari aurre egiten lagunduz sobre la pobreza energética ciertamente el sistema de protección social vasco responde a la pobreza energética por tres vías acuerdos firmados con las compañías eléctricas para evitar cortes de suministro a las familias que no pueden abonar las facturas

del que se benefician anualmente más de mil familias ayudas para paliar la pobreza energética dentro de las ayudas de emergencia social

recibieron ayudas para el pago de las facturas de gas y electricidad en este ámbito el cuestionamiento de zaldibar

decisiones ya adoptadas los propios gestores de la empresa han asumido su responsabilidad por el delito de homicidio imprudente y la juez determinará

por otra parte la unión europea determinó que el gobierno vasco había actuado con diligencia y efectuado los controles previstos en la normativa legal

primero rapidez para sofocar el incendio y estabilizar el vertedero garantizando la salud pública segundo

búsqueda de las personas desaparecidas tercero estabilizar el terreno y el vertedero cuarto reclamación a la empresa propietaria y responsable

quinto exigencia a la empresa del sellado definitivo del vertedero no hemos escatimado ni en tiempo ni en recursos económicos ni en medios materiales ni en humanos y he de decir que he

directos con aquellos que fue junto con los desaparecidos uno de ellos

lamento esta tragedia que nunca debería haberse producido y seguiré

con los familiares de las personas fallecidas en el bloque de empleo precariedad paro juvenil

es cierto que agosto no ha sido bueno en euskadi pero históricamente siempre ha sido así señor iturgaiz nuestro ciclo económico

no se corresponde con el ciclo económico turístico del estado en todo caso en agosto de dos mil diecinueve antes de la pandemia en euskadi había novecientos cincuenta y seis mil personas cotizando a la seguridad social y en agosto de este año

estamos como he dicho esta mañana a tres mil cotizantes de recuperar

aún no hemos recuperado todo el empleo perdido pero nuestra previsión sigue siendo recuperarla el próximo año

dirigido a cuatrocientos jóvenes con una oportunidad además del programa lehen aukera gaztelagun programa indartu dugu

edo hezkuntzaren sistemaren arrakastaz en relación a las mujeres creo que el acuerdo suscrito

la preocupación y la importancia que damos al avance necesario en lo que afecte también no solamente a lo que es la brecha salarial sino también a la discriminación

tenemos programas como morrokotudak para mujeres en sectores masculinizados por ejemplo el diez por ciento puede proceder también pero puede parecerle poco pero hace un año tan solo

de avanzar en un diez por ciento era una quimera afortunadamente hoy la realidad es otra fruto también de estas políticas públicas que se han ido

esta también sobre la mesa del foro de concertación de madrid de madrid el gobierno vasco está actuando

un observatorio para apoyar a las pymes y autónomos para que cuenten con el asesoramiento de osalan en esta materia el grupo de salud laboral por ejemplo de la mesa de diálogo social

cosa que también a la vicelehendakari segunda y a mí nos está preocupando por lo sucedido este verano en el que hemos visto un repunte especialmente trágico

con los agentes que ocupan su espacio en la mesa de diálogo social y el consejo general de osalan desberdintasuna areagotzea

la asociación estatal de directores y gerentes de servicios sociales ha concluido que los servicios sociales de euskadi

analiza veinticinco indicadores que recogen reconocimiento de derechos relevancia económica y cobertura efectiva algunos ejemplos gasto en servicios sociales por habitantes y año euskadi setecientos treinta y ocho españa seiscientos ochenta y ocho

euskadi el trece coma seis por ciento españa el nueve coma nueve por ciento cobertura de rentas mínimas de inserción a personas en umbral de pobreza euskadi el sesenta y tres por ciento españa el ocho por ciento plazas para personas sin hogar por cien mil habitantes euskadi ciento setenta españa cuarenta

mapa de la pobreza severa en españa y cito literalmente las cifras durante la pandemia entre dos mil diecinueve y dos mil veinte en euskadi las personas que se encontraban

en este mismo periodo en el conjunto de españa se incrementaron en ciento ochenta y ocho mil quinientos cuarenta y ocho personas en situación de pobreza severa estos son los datos

no son los datos y no nos conformamos estamos en pleno proceso para mejorar la renta de garantía de ingresos con el objetivo entre otros de que resulten más beneficiados los colectivos de pensionistas y familias con menores a su cargo

se ha mencionado también en relación con lo que es la afección de la crisis a las mujeres

y a la juventud creo que ya he mencionado también todo lo relativo a estas cuestiones

la información sobre el número de altos cargos y su coste está recogida en el presupuesto que aprueba este parlamento por lo tanto transparencia cien por ciento

son diecisiete personas más para gestionar el mayor presupuesto de toda la historia responder a la crisis sanitaria

y social más grave de las últimas décadas gestionar las nuevas competencias transferidas a euskadi además de todo el trabajo que tenemos que desarrollar como por ejemplo también lógicamente dar respuesta a la ingente cantidad de preguntas que se nos formulan por parte de los grupos parlamentarios el coste adicional es de uno coma tres millónes de euros sobre un presupuesto de doce mil cuatrocientos millónes ha hecho usted mención también

como el caso de las consultoras o el caso ope

el gobierno y las administraciones vascas son parte afectada el proceso judicial aún no ha concluido y es importante recordar que la sentencia no prohíbe

en las administraciones públicas el gobierno va a actuar siempre dentro de la legalidad hemos sido transparentes con este parlamento y con la justicia

todos los contratos realizados en los últimos años con las empresas investigadas y condenadas somos los primeros interesados en el esclarecimiento completo de estos casos en relación

siguen ustedes intentando encausar a los responsables políticos

a pesar de que la juez instructora ha decidido que no tienen ninguna responsabilidad y están liberados de toda sospecha de actuación irregular

creo que todas y todos tenemos una responsabilidad política y por lo tanto también aquellos

no he escuchado ninguna autocrítica tampoco en relación

a los procesos judiciales el gobierno ha actuado con transparencia y poniéndose en primera línea de la investigación hemos respondido por escrito y personalmente ante esta cámara a todas y cada una de las preguntas que ustedes han querido realizar hemos facilitado a la justicia todos y cada uno de los documentos y pruebas que nos han solicitado

colaboración y dejar actuar a la justicia respetar sus decisiones y pedir que se agilicen los tiempos al máximo para aclarar cuanto antes todos los hechos el gobierno ha tomado medidas para que este tipo de situaciones no se vuelvan a producir incorporando las aportaciones que hemos recibido para todo el proceso de oferta pública de empleo de osakidetza beste atal bat

de nuestro bien común y merecen nuestro común acuerdo

mi planteamiento responde al espíritu y los principios del programa de gobierno y creo que hemos de ser también rigurosos a la hora de interpretar lo que décimos en función de cuál es el compromiso

el compromiso suscrito dice el autogobierno es sinónimo de mayor bienestar para el conjunto de la ciudadanía el autogobierno su defensa y la reclamación de las competencias pendientes

sobre la base de los trabajos realizados por la ponencia parlamentaria de autogobierno en la pasada legislatura sobre estos principios se reafirma el compromiso para ampliar y mejorar el autogobierno de euskadi en base a los siguientes compromisos

el autogobierno hacia adentro defender el autogobierno alcanzado utilizando de forma efectiva los mecanismos políticos jurídicos e institucionales vigentes

por el cumplimiento de los compromisos políticos e institucionales asumidos para completar el autogobierno reconocido

conforme al cronograma de las posibles negociaciones en relación con los traspasos solicitadas por el gobierno de la comunidad autónoma del país vasco y sus posibles actualizaciones acordadas

el apartado veinticuatro de nuestro programa de gobierno he planteado un procedimiento de trabajo para avanzar en un nuevo pacto estatutario de futuro he propuesto términos métodos y conceptos ya expuestos con anterioridad en esta cámara he destacado la importancia

que es la interpretación actual de la realidad anterior a la abolición foral decía el señor hernández sigue sin estar presente mil ochocientos cuarenta y seis no he dicho mil ochocientos treinta y nueve el convenio de bergara

y mil ochocientos setenta y seis y sí interpretación actual de la realidad anterior a la abolición foral así está recogido en la disposición derogatoria segunda de la constitución

he planteado términos orientados al acuerdo mutuo reconocimiento bilateralidad efectiva sistema de garantía recíproco concertación política

que dé respuesta a las demandas mayoritarias de la sociedad vasca me he referido a la constitución y a la disposición adicional del estatuto se trata

flexible abierta y eficaz con los instrumentos legales con que contamos miren creo que vivimos un momento de oportunidad en el que deseamos superar un pasado de desencuentro

esta palabra encuentro es esencial la experiencia histórica el nuevo tiempo sin terrorismo y violencia el trabajo realizado en la ponencia

son razones para el encuentro merece la pena reflexionar sin demonizaciones ni entronizaciones apriorísticas con voluntad de encontrar puntos de acuerdo

y acordar no es claudicar si se quieren evitar conflictos e incomprensiones el principio fundamental que debe regular las relaciones políticas es

destacar lo que yo creo que nos une primero nos une europa

flandes suiza o escocia que permiten extraer lecciones conceptuales sugerentes para tratar de incentivar el debate y la reflexión en su proyección hacia la realidad sociopolítica vasca el modelo confederal de suiza

el modelo de reconocimiento internacional de flandes la dimensión europea nos debe ayudar a modular objetivos y precisar conceptos liberados de una rigidez que les convierte a veces en inútiles referentes totémicos que se agotan en sí mismos

solo pueden alcanzar su verdadero sentido en su proyección europea superando el siempre complejo

euskadi españa segunda cuestión que creo que nos une nos une un diagnóstico compartido apunto cinco

el estatuto no se ha desarrollado plenamente y no ha sido posible avanzar en todas las potencialidades del autogobierno

actualizar y adecuar el autogobierno vasco esta actualización debe realizarse desde el respeto a la singularidad vasca y el mutuo reconocimiento y creo que nos corresponde recuperar el espíritu de pacto y establecer un sistema de bilateralidad efectiva que garantice el cumplimiento de lo acordado sigue entroncando con la historia constatable

que construye o constituye el núcleo del procedimiento democrático reconocimiento de la capacidad de decisión y compromiso con el pacto político

y la voluntad de pacto en el seno de la sociedad vasca y con el estado y en este contexto

de su naturaleza pactada no se trata solo de discutir un listado de compromisos

a las competencias propias de un contenido también decisorio real pactar también su interpretación bilateral en caso de conflicto y garantizar el cumplimiento de lo pactado esto es lo anterior a la abolición de los fueros

y cumplimiento no quede al arbitrio de una de las partes toda solución ha de ser en última instancia un pacto con bilateralidad efectiva

creo que nos une la evidencia de la pluralidad y la voluntad política de avanzar desde el diálogo la negociación y el acuerdo el pacto en el seno de la sociedad vasca y con el estado

y sobre la que hemos construido nuestras dos experiencias estatutarias sobre esto hemos construido las dos experiencias estatutarias la de mil novecientos treinta y seis

constitución de mil novecientos setenta y ocho instrumentos capaces de facilitar ese nuevo pacto de convivencia la disposición adicional primera y la disposición derogatoria segunda y en virtud también de la disposición adicional única del estatuto de gernika

y una apelación a su posible actualización futura es decir lo que contempla el ordenamiento jurídico la constitución española el estatuto de autonomía en referencia a los derechos históricos es algo que porque obedece a una etapa anterior a mil ochocientos setenta y seis o a mil ochocientos treinta y nueve tenemos que desdeñar cuando hacemos referencia

pues el ordenamiento jurídico es esto lo que dice hay que volver a la vocación pactista como derecho histórico

en las relaciones euskadi estado y garantía de multilateralidad

territorios históricos y municipios en definitiva

hablamos en las conferencias de presidentes del estado español sobre que el estado español es un estado complejo es un estado compuesto

efectivamente de eso hablamos de que en un estado compuesto

complejo planteemos una gobernanza multinivel sobre una soberanía compartida merece la pena que hagamos el esfuerzo de profundizar en lo que nos une

la capacidad de alcanzar un nuevo pacto desde el mutuo reconocimiento y la bilateralidad efectiva merece la pena recordar que nuestros derechos históricos amparados y respetados puedan dar de sí tanto cuanto pueda alcanzar nuestra capacidad de lograr pactos institucionales

nos encontramos pues ante un punto de inflexión y una oportunidad para ofrecer a la sociedad vasca un mensaje positivo un mensaje de orgullo y de reconocimiento colectivo

un mensaje ilusionante la tarea que nos queda es inmensa ha llegado el momento de sumar fuerzas para la etapa de relanzamiento social y económico de euskadi

y no sobra la oposición tenemos mimbres para el acuerdo los he presentado esta mañana la negociación de los presupuestos del próximo año la tramitación de los proyectos de ley que se encuentran en la cámara los proyectos de ley de próxima aprobación

entre los grupos parlamentarios de la oposición y los grupos que sustentan al gobierno o al gobierno tenemos proyectos de especial relevancia para el futuro de nuestro país berpiztu euskadi next plan de ciencia tecnología e innovación agenda dos mil treinta reto demográfico

de seguimiento y de ejecución la sociedad tiene retos y oportunidades que exigen colaboración y esfuerzo común

que posiblemente la pandemia haya contribuido a acelerar estamos saliendo del túnel pandémico y tenemos una gran oportunidad con este pleno

le agradezco que públicamente nos haya reconocido como grupo mixto vox

y esperamos tomen nota el resto de los aquí presentes

vox ha acudido a sus convocatorias como habitualmente lo hace le hemos pedido valentía se acuerda reconozca que en este año

política nunca visto sí que es cierto que hemos acudido a sus convocatorias cuando nos ha llamado acudimos a la primera y mantuvimos un encuentro y además reconozco que muy cordial en el que solicité su apoyo para intentar eliminar este cordón antidemocrático a vox esperamos tres meses

se manifestó ni tampoco obtuvimos un atisbo de echar atrás eso por lo cual

y parte de ese cordón antidemocrático si realmente hubiera querido si esa hubiera sido su intención hoy vox podría defender sus postulados

sin sufrir violencia pero no es así ha preferido tratar como demócratas a quienes se resisten a renunciar a la violencia y nos apunta a nosotros usted y su partido nos apuntan a nosotros como culpables como los malos y a los que hay que apartar

voy a ser su conciencia se acuerda de la ley vasca del dos mil dieciséis la recuerda

no han sido siempre transparentes como usted acaba de relatar voy a seguir refrescándole la memoria

la va recordando esa ley fue recurrida por vox hace muy poquito y el tribunal superior de justicia del país vasco coincide con nosotros

vale pero esto no le ha sorprendido claro por eso sé que no le ha sorprendido porque usted sabía que esta ley era lo sabía ya desde el inicio y le digo por qué lo sabía se lo voy a contar también porque en dos mil dieciséis el gobierno del pp con mariano rajoy a la cabeza

pero claro solo amagó porque usted muy hábilmente pactó con el pp para que mariano rajoy desactivara el recurso y usted a cambio apoyaría con sus votos los presupuestos del gobierno de españa voy bien encaminada verdad

nosotros no vamos a andar ni vamos a entrar en ese tipo de juegos no vamos a reunirnos para disputarnos la bolita dónde está la bolita no lo vamos a hacer la bolita señor urkullu está para servir al ciudadano y no para traicionar a los votantes

honestidad y palabra palabra con los nuestros y honestidad de no llegar a acuerdos que no vamos a cumplir recuerda su pacto con el pp ahora

a cambio de presupuestos generales del estado la palabra

pues una vez obtenido su beneficio votó a favor de la moción de censura contra mariano rajoy traicionando así a su interlocutor

no amaga hemos denunciado y le hemos ganado de momento hemos subsanado esa gran traición por otro lado nos acaba de acusar de que defendemos españa la centralidad es evidente que el país vasco está en españa creo es una comunidad que está dentro de españa vamos a situarnos sin embargo ustedes hablan de euskadi

dentro de europa creo que están muchísimo más descentrados ustedes porque tienen que reconocer que euskadi no es un país y menos dentro de europa por eso este debate señor iñigo urkullu es el debate de política general no el debate de la nación como a usted le hubiese gustado

lehendakari jauna he comenzado usted ha comenzado esta tarde con más humildad

y sus agujeros negros en algunos casos de su gestión y luego hemos visto que al avanzar

se ha ido para arriba y le ha podido eso de la autocomplacencia que parece que no le gustaba mucho pero por supuesto que todos somos conscientes del carácter generalizado de la pandemia y de las dificultades no se lo ponemos en duda pero cómo se afronta la pandemia es lo que le diferencia a unos gobiernos de otro yo escuchándole esta mañana y parte de lo de la tarde señor urkullu nos debemos dar cuenta que somos

que el mapamundi empieza y acaba en euskadi escuchándole a usted y la verdad es que yo no puedo entender cómo de más países del globo terráqueo u otras comunidades autónomas no siguen sus pautas y sus proyectos creando

que como usted dice además berpiztu con solamente una vez reunidos es el nuevo renacimiento ya tela porque como le decía anteriormente yo no salgo del asombro cuando usted nos dibuja un oasis vasco

como le he explicado en mi intervención yo creo que hay mucho marketing hay mucho renombre y

porque los problemas son muchos y son graves en todos los órdenes en todos los órdenes en nuestra sociedad usted se ha atrevido incluso a decir aquí esta mañana

que más ayudas ha dado a varios sectores y ha citado a la hostelería como ejemplo

es curioso que no se ha debido de enterar de lo que usted dice hoy aquí

con usted y con su gobierno es mayúsculo por el sector hostelero y sigue siendo mayúsculo y nos lo dicen todos los días desde ese sector en esta sociedad

una pandemia sanitaria una pandemia económica por cierto todas esas industrias que usted hoy ha comentado aquí son sector privado me alegro como usted de que tengan esos éxitos pero

lo que tiene que hacer se atribuye esos éxitos de la iniciativa privada

los que necesitan ayuda son las pymes son los autónomos también y usted no habla mucho de ellos

y tenemos una pandemia social y una falta de libertad muy preocupante y muy grave lehendakari

agian ahaztu zaizu edo ez dakit zer pero sin duda alguna simplemente le he dicho le he comentado ese olvido que usted ha dicho que no lo ha citado que por supuesto por privado y por público como le he dicho le di las gracias

lehendakari jauna por eso también quiero decirle que yo creo que hay que pisar el suelo

y lo que representamos y valorar su mala gestión en muchos puntos

el noveno país en otras en la defensa de algunos sectores hemos descubierto que en esa clasificación europea de la unión europea

la baja del reino unido con el brexit lo toma euskadi nosotros ocupamos ya el veintiocho ya somos un país como le decía la señora martínez y las regiones o comunidades autónomas que a usted le gusta citar flandes u otras comunidades o las que no cita

no son partícipes de esa clasificación porque solo caben los veintisiete y euskadi y euskadi bien

cuánto mejor haríamos lehendakari si cuando hablamos de europa ayudaríamos más a españa a ser más fuerte porque si

nos irá bien a nosotros nos irá bien a los vascos ahora si usted quiere jugar

por formar parte de españa y si usted se inventa clasificaciones como país de la unión europea pues seguiremos errando en el caminar europeo y hablando de europa

como sánchez su socio le esconde los fondos europeos seguimos a día de hoy y ustedes nos lo dicen sin saber ni cantidades ni adjudicaciones ni plazos ni nada de eso y yo no sé si usted también juega al escondite con ello como sánchez pero aquí

mire lehendakari en su discurso también esta mañana ha hablado del auto del tribunal superior de justicia del país vasco sobre el auto del aforo de los estadios usted y su gobierno tienen un problema con la justicia y con los jueces y todo viene y permítame que

porque usted en determinados temas se ha puesto a recibir en el albero al morlaco a puerta gayola y el morlaco al salir

que le ha mandado a los tendidos con seis cornadas señor lehendakari

varapalos que usted lehendakari y su gobierno han recibido y usted nos dice primero respeto a las decisiones muy bien segundo que toman decisiones

y yo le pregunto lehendakari si hoy estamos en este recinto cerrado aquí sin ventanas pequeño y estamos el cien por ciento de la capacidad con diputados invitados funcionarios letrados cómo vamos a impedir

no pueda haber el sesenta por ciento de la capacidad del estadio oiga

y un doble rasero lamentable no es razonable esas críticas a la justicia

y también le digo que los tribunales cuestionan las medidas las medidas de un grupo según usted es muy científico tan científico que está encabezado por el señor jonan fernández

a las decisiones judiciales que usted decía esta mañana en la tribuna

sobre el aforo usted cree que es respeto el comunicado del euskadi buru batzar de su partido me dirá usted que no es que eso es el partido y usted es el gobierno sí pero es su partido

lo leo literalmente el euskadi buru batzar lamenta la falta de adecuación de parte de los magistrados a la realidad de este país porque no son de aquí

esto no es respeto a las decisiones judiciales permítame que se lo diga así aquí algunos nos preguntamos la justicia válida cuál es la que dicta el euskadi buru batzar en sabin etxea yo sé que sabin etxea está a pocos metros del palacio de justicia

del palacio de justicia sino usted quiere ser los caseros del palacio y los caseros de sus componentes en ese palacio de justicia y usted ha hablado esta mañana también del autogobierno bueno no sé si tendremos que aquí algunos ponernos ya pues la txapela de carlistas

y sus postulados y sus posiciones yo cuando echo una mirada a la cámara en este asunto del autogobierno más o menos

dicen que quieren un estatus para la independencia y la soberanía clarísimo los de podemos hoy nos hemos enterado un estatuto republicano federal la señora martínez de vox

los socialistas quieren algo con corte federal y modelo federal

nosotros queremos y defendemos nuestro estatuto de gernika y nuestra constitución española y llega a su turno señor urkullu y su postura se lo digo con todo afecto y no se lo tome a mal su posición al respecto me recuerda a esos bailarines turcos los derviches

y cuantos más vueltas dan no se mueven absolutamente nada pero hay un momento que esos derviches

porque tienen que comer tienen que dormir tienen que hacer sus cosas y usted señor urkullu que da vueltas a este asunto con floritura

tendrá que parar en algún momento y decirnos dónde está y dónde claramente quiere situarse porque hoy hemos vuelto a escuchar en una nueva vuelta de tuerca

del concierto político no podemos plantearnos el futuro

falsedades lehendakari usted ha apelado a la realidad histórica y la verdad es que usted ha presentado una ficción histórica mire al reclamar usted la soberanía anterior a mil ochocientos treinta y nueve o de esos años yo les quiero recordar

como lo es ahora y con su propia soberanía no había entonces soberanía

soberanía que dice usted residía en cada provincia sin que hubiera un país vasco ni un gobierno vasco

en tercer lugar ni las elites políticas ni las económicas planteaban nada al margen o fuera de españa no había vascos había vizcaínos y españoles alaveses y españoles guipuzcoanos y españoles y yo le digo también

que si se apoya usted en la mitología nacionalista no hubo ninguna soberanía foral antes de mil ochocientos treinta y nueve ni antes del mil ochocientos doce después de dos siglos de contraposición de constitución y fueros

en nuestra ley fundamental y el concierto económico y por lo tanto es tal su alejamiento de la realidad que considera concierto como imposición

que ya fue derogada por la constitución le leo disposición disposición de la constitución en el segundo apartado en tanto en cuanto pudiera conservar alguna vigencia se considera definitivamente derogada la ley de veinticinco de octubre del mil ochocientos treinta y nueve

en los mismos términos se considera definitivamente derogada la ley de veintiuno de julio

por lo tanto usted no plantea una reforma del estatuto lo que está planteando es una ruptura de la constitución española porque ustedes quieren un concierto político que signifique no más autonomía sino soberanía señor mire termino ya en mil ochocientos treinta y nueve

usted sabe gobernaba en españa isabel segundo de borbón

el magistral escritor la denominó la de los tristes destinos no siga esa senda señor urkullu de los tristes destinos para euskadi con sus decisiones en el estatus y en su concierto político este año nos tocaba

diecinueve usted ha hablado ha traído aquí a

yo no sé si con un poco de suerte el año que viene nos va a llevar al paleolítico
con los derechos forales de aquellos tiempos amaitu mesedez no sé igual tenemos un poco de suerte pero sin duda alguna
señor urkullu yo creo que de verdad la ficción

en aventuras para el país vasco para la sociedad vasca porque no estamos para aventuras eskerrik asko

el segundo turno de intervención el lehendakari diciendo que quería dar una visión positiva de la acción de gobierno y que sin embargo la intervención de la oposición

erronkak hartzea claro dice también que ha reconocido las sombras

no debería consistir en hacer una descripción de los sufrimientos varios para describir los sufrimientos varios vale cualquiera

de un gobierno cuando hace referencia a los sufrimientos varios consecuencia de una pandemia no es tanto que los describa sino que se plantee qué es lo que

se ha hecho mal o qué es lo que se podía haber hecho mejor y en este sentido había cosas que se podían haber hecho mejor

a otra cuestión que nos ha dicho el propio ararteko nos está diciendo con respecto a la pandemia que retomar la atención presencial en las administraciones públicas y de toda índole no es una cuestión a abordar de forma gradual sino que debe adoptarse de forma

también sabemos y se nos dice que estamos yendo tarde muy tarde

y en el caso de la salud además que se está traduciendo en diagnósticos tardíos

claro por qué pasa todo esto por qué vamos tarde por qué nos cuesta tanto

normalizar las cosas bueno pues yo aquí sí quiero decir que es porque efectivamente de un tiempo de recortes en los servicios públicos y desatención de los servicios públicos y de la privatización de los servicios públicos en este sentido me decía también que había una serie de contradicciones en las cosas que yo estaba diciendo yo creo que aquí hace un poquito la trampa del

de coger esto que me gusta que queda bien ocultar estos otros datos que quedan mal y claro eso no nos ofrece una fotografía un relato verdadero y objetivo de cómo es la evolución de las cosas

las inversiones públicas o las políticas públicas claro si vamos

públicos si atendemos a años al año anterior por ejemplo es posible que sí que haya habido alguna subida

y si cogemos además no tanto cantidades así sueltas abstractas y sin más sino las enlazamos con datos de pib pues seguramente seguramente y si los

pues seguramente la fotografía el relato que sale no es tan halagüeño y realmente los recortes están

egia da si miramos a la constitución es cierto que los derechos históricos se

la actualización de los derechos históricos se reconoce en la constitución pero se reconoce con un objetivo muy concreto y es posibilitar el desarrollo de un sistema autonómico que pudiera ser especial en este caso para nosotros para euskadi

somos una comunidad autónoma especial y

no es tanto que se haga referencia a ese elemento de legitimidad jurídica

sino que desaparece o se neutraliza de alguna manera la importancia que tiene cuando hablemos de autogobierno de nuevo estatus o de lo que haya que hablar

lo único que nos debiera importar y eso es lo único que nos va a importar a elkarrekin podemos izquierda unida cuando hablemos

réplica aunque parezca curioso dándole la razón en una cosa que ha dicho la portavoz del grupo

es verdad que a cada cosa hay que llamarle por su nombre a la xenofobia hay que llamarle xenofobia

homofobia a la violencia machista hay que llamarle asesinatos machistas contra las mujeres al odio hay que llamarle odio a vox hay que llamarle ultraderecha y aquellos que predican el discurso del odio hay que llamarles responsables de toda esa violencia y como ha hecho una referencia a las uñas de los socialistas que dice que las traemos cortadas le diré que bueno que entre otras cosas tenemos un sentido de la higiene

a pesar de que eso no entre dentro de sus estereotipos de masculinidad

el sector hostelero además de haber estado muy castigado ha estado desatendido en fin permítame que discrepe porque creo que ha sido un sector que ha estado perfectamente atendido con más de cien millónes de euros en ayudas y que ha contado con un extraordinario aliado en la figura del señor y ha hecho una apreciación si a españa le va bien a euskadi también

pero es que cuando a euskadi le va bien a españa también le va a ir bien

ambas instituciones españa y euskadi colaboren y trabajen por el bien común de todos

del comodín del en fin del catastrofismo es verdad que algunos en fin han venido con ese catastrofismo

y otros como nos vienen acostumbrando en el último año y medio han venido con el comodín de nosotros solos lo haríamos mejor

que eh bildu siempre durante este último año y medio ha intentado dar la impresión de que tenía la fórmula secreta contra la pandemia y la fórmula secreta contra la pandemia consistía básicamente en llevar la contraria al gobierno vasco esa era la fórmula secreta para salir de esta pandemia ahora tienen otra fórmula para mejorar el mercado laboral otra para las pensiones otra para la educación para acabar con el calentamiento global para cambiar el mundo en fin para todos

soberanía no hay otra fórmula la única fórmula es soberanía y yo les digo que eso es

error están empeñados en dar una impresión catastrofista sobre todo lo que se mueve por cuestionar todo lo que se hace para única y exclusivamente

profundizar en lo que verdaderamente importa a la ciudadanía vasca mire yo le respeto profundamente yo entiendo que tanto ustedes como ustedes

y defenderlo porque es perfectamente legítimo y es muy respetable porque para eso estamos en democracia evidentemente no esperen que nosotros lo hagamos pero lo que no pueden intentar es que a través de una reforma del estatuto construyan una gatera para colar lo suyo porque eso no eso es hacer trampa

que hemos conquistado durante estos últimos cuarenta años en los que están por venir en construir la base para lo que tiene que ser el futuro de euskadi por qué no nos centramos en lo que nos une y ponen ustedes tanto el acento en lo que nos separa por qué no centramos todo nuestro esfuerzo en construir esa euskadi del futuro a través de una reforma del estatuto

que saben de inicio que nos van a dividir a los vascos vamos a resolver los problemas en vez de a crearlos que es para lo que nos quieren los ciudadanos para resolver los problemas

no para crear además un debate que creo que en estos momentos en estos precisos momentos no está entre la ciudadanía vasca

a la vasca porque ya sabemos cuál es el resultado como otros resultados que hemos tenido

que creo que es mucho más proactivo y mucho más constructivo en fin nosotros nuestro modelo ya que se nos ha interpelado lo tenemos muy claro y ese modelo pivota en dos premisas respecto a la legalidad

y creo que sobre esas dos premisas tenemos bastante más que construir que

yo creo que a veces es mucho más importante saber quién es capaz de acordar y que no se puede o no se debe hacer política de trincheras creo que es algo

el ir unos contra otros creo que no contribuye para nada a construir una sociedad cohesionada que transmita esa sensación de tener todos ese objetivo de conseguir una sociedad en igualdad se han puesto datos aquí encima de la mesa en torno en fin

los suyos yo voy a poner los míos y es que hay datos hay estudios

pero un cuarenta y uno por ciento en contra y que hay tan solo un diecinueve por ciento de la ciudadanía vasca que se siente exclusivamente vasca oiga echen cuentas

fundamentales primero porque un referéndum contra otros sería una vez más volver a dividir

que hemos construido durante los últimos años y segundo porque eso está fuera de la ley y nosotros los socialistas vascos nunca nunca nunca vamos a ir en contra de algo que está

interpelación le diré que en fin que su discurso

qué opinará de sus palabras ha dicho ya sabemos cuál es el modelo del señor andueza y de los socialistas que la mayoría

no está usted muy equivocado que la mayoría que el conjunto de la sociedad se someta a lo que dice la ley a lo que dice nuestro marco legal que entre otras cosas es

y que la mayoría se someta al respeto a la pluralidad y a la diversidad que está presente en este país en euskadi eso es lo que he dicho y en eso tengo el pleno

esta sociedad yo sí le preguntaría y la pregunta es muy sencilla podemos utilizar todos los términos todos los juegos de palabras que queramos

mi pregunta a usted es clara es concreta y se puede responder con un sí o un no el partido nacionalista vasco está a favor de la independencia sí o no respóndame

hori da nire eskaintza en fin yo evidentemente no soy quien para decirles

al siglo dieciséis al diecisiete o al diecinueve yo solo le voy a decir que el partido socialista los socialistas vascos

este gobierno mira al futuro y mira con esa óptica de estar construyendo los retos de futuro

en el siglo diecinueve iriarte andrea interpelazio

beraiei egitea miren nosotros no nos vamos a cansar de denunciar que esos hechos son lamentables desde un punto de vista ético y moral

los homenajes suponen una humillación a las víctimas en una sociedad sana como esta y después de diez años del fin de eta creo que esas cosas

muy directa sobre eso y creo que deben de ser valientes creo que deben de ser valientes y que deben de poner fin a esas cosas

o esos recibimientos los hagan ustedes en el ámbito privado de su familia pero hacer una ostentación

a una persona por ejemplo que ha generado cuarenta asesinatos me parece tremendamente grave tremendamente grave

y me voy a adelantar por si acaso tienen ustedes en fin la tentación de decirnos

hemos condenado todas las violencias se llamen cómo se llamen vinieran de dónde vinieran y estuviera detrás quién estuviera

siempre siempre siempre en un ejercicio muchas veces

les pedimos esa misma honestidad esa misma valentía que ustedes condenen que se quiten esa mochila que reconozcan

no sirvió para nada y probablemente el día que lo hagan

para construir la euskadi del futuro eskerrik asko eskerrik asko andueza jauna

irabazi nahi dugulako eta claro aquí viene la trampa que ayer también el señor sánchez coge la frase

y suelta aquello de vivimos juntos tenemos que decidir juntos ibarretxe contestó en la cámara tenemos que poder decidir vivir juntos

ahí está la clave claro dices que no claro para ti

no surge ni un mandato democrático no digo que coincidáis no surge ni un mandato democrático

en el sentido de querer una nueva relación un nuevo estatus mayor autogobierno no os urge ni una obligación democrática

esto están planteando habrá que dar un encaje porque de lo que se trata

no de coexistir que ya estamos coexistiendo coexistiendo es sobrevivir a los efectos políticos

y si vas a un marco de convivencia desde el respeto a los derechos de las naciones y pueblos

un marco de convivencia esa es la verdad

los límites del desarrollo político económico social y cultural de nuestro pueblo los tienen que definir y decidir los vascos y las vascas y después negociar

y pactar pactar no consensuar que el consenso es el acuerdo por consentimiento y pactar supone obligación en el fondo con las garantías y obligaciones

dice iturgaiz las antiguallas etcétera etcétera no le voy a hablar de la

como españa me voy a remitir a los fueros y le voy a leer una expresión una disertación de jose antonio agirre el lehendakari que hace suyas las palabras de altzibar

porque parece que esto de los fueros es una antigualla algo que han sacado estos del desván de la historia dice fuero quiere decir libertad facultad soberanía será foral todo aquello que el pueblo por su voluntad sin que esté obligado a someterse a lo que fue voluntad del pueblo de ayer la esencia del fuero no está en la historia de su existencia

autodeterminación en todo tiempo lo que el pueblo quiera y lo que quiera hoy foral no es una determinada ley sino todas aquellas que el pueblo vote con sujeción a su modalidad democrática hori da